javier ruiz de arbulo cerio euskal talde popularreko legebiltzarkideak egindako mozioari dagokionez

convencimiento de que esta propuesta de ley tiene que ser la definitiva después de diversos intentos de traerla a esta cámara establecimos cuando la ley de puertos a la cámara y cuando la presentamos en septiembre el objetivo de lograr un acuerdo que nos permita dotarnos de esta ley de puertos y transporte marítimo del país vasco en cuanto a los objetivos

aplicable a los puertos e instalaciones portuarias y marítimas regular la gestión del dominio público portuario

regular el régimen económico financiero derivado de la utilización del dominio público portuario y de la prestación de los servicios portuarios

la actividad del transporte marítimo de pasaje de mercancías y del transporte mixto en aquellos puertos que son competencia de la comunidad autónoma del país vasco y establecer así mismo el régimen sancionador en el dominio público portuario así como potestades de

además cabe señalar que la ley prevé un consejo municipal portuario que es un instrumento de participación institucional y también social para articular

entre la administración portuaria y las administraciones municipales que son responsables en cada uno de los municipios portuarios de aquellas actividades que están de alguna forma en conexión con el puerto se apuesta por una convivencia

y hay que señalar que también otros aspectos normativos que hoy voy a citar son el de la ordenación portuaria

que son los planes especiales de ordenación de cada uno de los puertos que regulan el uso urbanístico que van a tener delimitación de los usos y espacios portuarios con

así mismo se establece el régimen jurídico en cada uno de los puertos de euskadi que

las distintas actividades y usos que se desarrollan en los mismos y que confluyen en el mismo espacio portuario se establece también un registro de empresas un registro de empresas operadoras en el transporte marítimo

de mercancías y las de uso mixto es un registro informativo que a los efectos se utiliza para dar publicidad y que define el contenido

horarios y periodo de prestación de servicio embarcaciones y sus características las tarifas y otras condiciones económicas

un régimen de policía y régimen sancionador que

con el ejercicio de potestades de desahucio de recuperación de la posesión

a un principio de legalidad y con la tipificación de las diferentes infracciones se establecen aquellas que son leves las graves y las muy graves asimismo

de la regulación relativa a las tasas portuarias incorporando una completa definición de las mismas y la restructuración de algunas de las actualmente existentes

en esta cámara desde luego suscitaba un problema en la presentación de la ley anterior era el de la referencia a la constitución del ente

y en estos momentos hemos presentado además atendiendo a esa voluntad que existe en esta cámara una enmienda en la que se dice lo siguiente

desarrollará y ejercerá la política portuaria de la comunidad autónoma del país vasco con las mismas funciones que tiene actualmente y prueba de ello además es que

la dirección de puertos y asuntos marítimos en el propio departamento es decir la administración y el desarrollo de toda la competencia en materia de puertos y asuntos marítimos

en el nuevo ente se plantea asimismo en esa enmienda modificar la naturaleza jurídica de la sociedad pública euskal kirol portuak en este momento es una sociedad pública anónima como ustedes sin duda conocen con la nueva propuesta adquiriría la naturaleza jurídica de ente público de derecho privado para cambiar el objeto se dice textualmente en la enmienda que con el mismo objeto y funciones que actualmente tiene esta sociedad pública con el fin de aglutinar y dar un poco de coherencia a todas las instituciones portuarias

que es mejor que esta sociedad pública actual se convierta en un ente porque en estos momentos si la convertimos en un ente público de derecho privado

al ejecutivo con potestades administrativas queda en el ámbito de la administración administración pública cosa que no ocurre si es una sociedad anónima y todos los elementos de limitación de control presupuestario de intervención en todas las actuaciones dedicadas

quedan perfectamente asimiladas a lo que es una administración pública y dentro de la estructura del propio es mucho más garantista un ente público de derecho privado que una sociedad anónima y así lo hemos entendido y lo hemos establecido en esa enmienda que hemos presentado todos esos aspectos por tanto quedarían dentro de la administración pública del gobierno vasco

no modificamos ni el objeto ni en ningún caso las funciones que tiene en estos momentos pero le damos una coherencia de gestión a todos los puertos que he citado

cosa que se está demostrando que está dando muy buenos resultados es decir trabajar en todos los puertos con unas mismas estructuras y un mismo modo de funcionamiento hace que la gestión portuaria esté llevando a unas condiciones mucho mejores que las existentes previamente

y estableciendo ese paso de sociedad pública a ente público de derecho privado entendemos que el funcionamiento va a ser mucho mejor

esos son los objetivos de la ley las modificaciones que presentamos

la gestión administrativa pública dentro del gobierno queda perfectamente garantizada y con la conversión de la sociedad pública en un ente también entendemos que la gestión

de la propia administración y esas garantías quedan perfectamente establecidas eskerrik asko eskerrik asko tapia

esta decisión del departamento constituyendo un nuevo ente llamado además a ocupar una posición angular en la configuración del sistema portuario vasco

y justificación de las razones que avalan su adopción que no encontramos en la exposición de motivos del anteproyecto ni en la documentación anexa al mismo este requerimiento es a ese juicio de este consejo especialmente importante

por una parte es necesario un esfuerzo y cautela para evitar la proliferación de estructuras administrativas que conduzcan a sobredimensionamiento duplicidades e ineficiencias en segundo lugar ante la ausencia de una legislación vasca con criterios

su propuesta de idoneidad debería justificarse al menos en términos de eficacia y de eficiencia y por último lugar el calado de la decisión relativa a la creación de kaiak

un plan económico y una proyección de sus presupuestos para un plazo de cinco años entendemos que el estado actual de la redacción del anteproyecto de ley

no justifica la forma jurídica adoptada por el mismo

la incorporación al mismo de los elementos a los que hemos hecho referencia en este apartado kontrol lege ekonomikorako bulegoaren iritzia ere

baina aipatzen dituenetatik azpimarragarriena hurrengoa da no facilita datos que justifiquen suficientemente que la fórmula que plasma el proyectado decreto

para asegurar una más eficaz y eficiente ejecución de la política departamental en la materia

que coincido con usted en el inicio del texto en su enmienda a la totalidad en que

que han tenido los diferentes gobiernos de aprobar una ley al respecto y espero y deseo que esta sea la definitiva no espero y deseo estoy convencido que esta va a ser

pone de manifiesto esa competencia se hizo real en virtud al real decreto novecientos barra dos mil once del veinticuatro de junio y en fin teniendo

regule y que nos permita gestionar debidamente esta

una competencia que es la competencia de los puertos de interés general de momento tenemos la competencia que tenemos vamos a regularla eta gero gerokoak

y sí evidentemente vemos necesaria una regulación que ordene algo una cuestión que está actualmente

el objeto de la ley queda claro queda perfectamente definido observamos que es perfectamente necesario y además yo creo que ya nos empieza

pero me ha dado la sensación que su enmienda a la totalidad está absolutamente sustentada en el texto anterior me da la sensación que usted ha hecho caso omiso no solo a la comparecencia que en su momento realizó la señora tapia la comisión correspondiente y que además ha hecho caso omiso a las enmiendas presentadas como decía por los grupos que sustentamos al gobierno yo no le voy a ocultar que si de mí hubiera dependido quizá la tramitación hubiera sido

no hubiera variado mucho creo que urge como decía por tanto había que intentar un camino que de laguna manera no nos devolviera inicial y volviera a retrasar la tramitación de esta ley qué quizá hubiera sido igual de rápido que los grupos que sustentamos al gobierno hubiéramos presentado una proposición de ley no se lo voy a ocultar pero no es menos cierto que en cuanto a recorrido que en cuanto a tiempos en fin

lo perfectamente suficientes para que todos tuviéramos en cuenta o nos diéramos cuenta de la dimensión de la cuestión cuál era la voluntad del gobierno y por tanto quedaba perfectamente clara esa voluntad y ese recorrido por tanto una tramitación ordinaria creo que hubiera retrasado mucho más

cuál era el objeto y el camino a seguir y en gran medida su enmienda a la totalidad pivota sobre la cuestión de kaiak y la ha dedicado un montón de tiempo a darle vueltas al tema

es decir bien es cierto que el texto de la ley lo dice pero no es menos cierto que la señora tapia puso de manifiesto

de descartar ese ente y es más como lo repetía si ha tenido usted ocasión de analizar de manera pormenorizada las enmiendas presentadas conjuntamente por el grupo parlamentario socialista y el grupo parlamentario nacionalistas vascos habrá observado que kaiak queda absolutamente descartado por tanto los argumentos que ha puesto encima de la mesa entiendo que no son válidos

pero no tiene ningún sentido a la vista de la voluntad expresada por la señora consejera y de esas enmiendas ya registradas

apuntan en su enmienda a la totalidad que es posible una gestión directa y así lo ha entendido también el gobierno

que haciendo una diferenciación de los diferentes puertos de las diferentes característica que tienen los puertos con los que contamos en euskadi

maneras que la gestión pública que en su momento estaba derivada al ente

ya está asumido es la apuesta que hace este gobierno es la apuesta que hacen

sustentan y así queda de manifiesto en esa enmienda a la totalidad por tanto

carga contra ekp que luego volveré sobre la cuestión

que el tiempo ha venido a darnos la razón nosotros

así va a ser a tenor de nuestro criterio y a tenor también de cómo usted bien ha apuntado lo expresaron los diferentes entes

los diferentes movimientos sociales que vinieron a comparecer durante la pasada legislatura y que han mantenido ese mismo criterio aquellos que han comparecido en comisión

misma legislatura como le decía en su propia enmienda a la totalidad hace referencia al posicionamiento de mi grupo parlamentario durante la pasada legislatura se habrá dado cuenta que no nos hemos movido ningún ápice al respecto no no

y a partir de aquí pues en buena medida el futuro de esta ley dependerá de los acuerdos a los que lleguemos durante la tramitación durante la aprobación el debate de las enmiendas presentadas no me cabe ninguna duda que en esa cuestión no creo que tengamos mayores problemas a la vista de lo que usted ha expresado y a la vista de que coincide con nuestra visión pero bueno para evitarle alguna duda ustedes se preguntaban en su enmienda a la totalidad gestionará la administración directamente los puertos de pesca y mercancía y un ente público de derecho privado los puertos deportivos y de ocio la respuesta es

dependiera sí cómo se garantiza la gestión integral pues yo entiendo que pueda haber mecanismos de coordinación entre administración

a permitir entiendo que no existe ninguna dificultad para que eso sea así y además se lo ha explicado perfectamente la señora consejera en su intervención

se incorpora una cuestión que a nosotros nos parecía fundamental y que va a ser posible si verdaderamente todos los grupos así lo estimamos o una mayoría parlamentaria estima en tanto en cuanto se van a crear unos consejos municipales que también permitirán coordinar mucho mejor a la administración

público de derecho privado que en el que se convertirá euskal kirol

entendemos que las características las especificidades la gestión y la dimensión

mezclar kaiak con euskal kirol portuak no tiene ningún sentido porque no tiene absolutamente

absolutamente nada que ver y se lo ha explicado perfectamente la señora consejera es decir asimilar lo que ahora es una sociedad anónima con lo que va a convertirse

que adquiera ahora mismo esa condición que la condición que tiene actualmente cobra todo el sentido del mundo es infinitamente

el control y la gestión dependen directamente de alguna manera administración por tanto creo que viene a darnos la razón en buena medida dentro de los argumentos que usted ha puesto encima de la mesa yo creo que el objeto no tiene por qué variar va a tener unas competencias determinadas va a tener un objeto determinado y va a tener unas características un régimen jurídico determinado pero que es un régimen jurídico que como le decía va a permitir que la administración tenga un control directo sobre ese ente público a pesar de que sea de derecho privado por tanto entendemos

garantista hablaba usted de las tasas pues mire el control habida cuenta de que la especificidad jurídica de ese ente va a variar

va a ser mucho más directo la administración va a poder controlar mucho mejor y va a poder fiscalizar

por tanto en fin yo creo que en nuestras enmiendas si ha podido observarlo creo que las funciones las competencias el control quedan perfectamente definidos en sus manos estará aprobar o no o hacer posible que eso sea así yo creo que puede ser así y yo creo que de alguna manera ustedes y nosotros no estamos

tan lejos no estamos tan lejos ha puesto encima de la mesa

a la gestión que creo que es adelantarse bastante bueno yo creo que lo primero lo prioritario es aprobar esta ley que seamos capaces de hacer una ley eficaz

de la mayoría de esta cámara y a partir de ahí veremos cómo se gestiona pero creo que a través de las enmiendas que hemos presentado queda perfectamente

claro que esa gestión puede ser mucho más eficaz que puede ser mucho mejor y que además es la voluntad del propio gobierno por tanto habida cuenta de que nuestras

descartamos absolutamente la creación de un ente como kaiak que definimos a la perfección cuál es el objeto cuál es la razón jurídica de euskal kirol

encomiendas y cuál puede ser ese modelo de gestión y que va a tener una vinculación directa con la propia administración no le veo mayores problemas para que ustedes

queda de manifiesto la creación de esos consejos municipales que como decía pueden ser una herramienta que van a ayudar muchísimo más a que esa coordinación entre entes

fuerte y además nos permita a la administración poder tener conocimiento mucho más directo de las problemáticas no en conjunto de los puertos sino

uno de los puertos que tenemos en euskadi a través de esos consejos municipales creo que esta ley no solo viene a ser más que necesaria sino que creo que va a cumplir con las expectativas que todos y todas tenemos sobre ella eskerrik asko

aurka egiteko si uno lee y no necesariamente con atención el texto presentado para la enmienda

ante el mismo proyecto de ley presentado en la anterior legislatura y así dicho

pero es necesario dar algunas explicaciones y establecer algunas precisiones que hacen

el mismo día de la presentación de este proyecto por parte de la consejera de desarrollo económico e infraestructuras ante la comisión correspondiente exactamente el catorce de septiembre de dos mil diecisiete

por circunstancias diríamos de economía procesal el gobierno había optado por remitir al parlamento el mismo proyecto que había remitido aunque solo unos meses antes

se produjo una inicial sorpresa que en la segunda frase de la consejera se alivió

sabiendo que se trataba de un tema concreto estaba dispuesta a solventarlo kontua argitu genuen aurkezpenean eta horren ondorengo bilkura

en vez de optar por rehacer una ley nueva y rehacer los infinitos trámites que requiere se optó ya que era una ley muy debatida con anterioridad por remitir una ley

de hecho el último en intervenir en aquella sesión fui yo mismo con las siguientes palabras y abro comillas por cierto enmiendas que ya las tienen en sus ordenadores ya las tienen y por tanto en estos momentos las estamos compartiendo todos y espero que como desde el minuto uno ya estamos compartiendo las enmiendas

es decir nuestras enmiendas al menos en lo que a modificaciones sustanciales de la ley tienen estaban a su disposición desde el catorce de septiembre pasado es decir

lo que en general se ha producido en casi todos los grupos que han presentado una importante batería de enmiendas parciales salvo eh bildu que se ha reiterado con la enmienda a la totalidad

aunque en su argumentario carga esencialmente y hoy lo hemos visto también en su exposición oral contra la creación del ente público kaiak no podría ser en sí mismo una enmienda a la creación del ente público kaiak

digamos que es una enmienda preventiva por si lo que habíamos afirmado públicamente a todos los grupos parlamentarios no lo cumplíamos

no las presentábamos por si éramos unos mentirosos unos tramposos es una enmienda de desconfianza y si alguien empieza las cosas con desconfianza

aprovecho para agradecer al resto de grupos que no han reiterado sus enmiendas a la totalidad la confianza mostrada en nuestro grupo y el grupo socialista creyendo que aquello que dijimos pues lo íbamos a cumplir como así ha ocurrido lo hemos cumplido lo que me lleva a pensar que podía haber sido una buena oportunidad para que eh bildu

se ve que siguen desconfiando y pensando que probablemente puede ser que volvamos a retirar las enmiendas de hecho la enmienda

así como informes de la comisión jurídica asesora o de la oficina de control económico que no encontraba el suficiente justificación a la creación de kaiak pero

kaiak pero la propia enmienda que insisto copia del anterior en sus últimos párrafos se amplía de la primigenia para indicar que

se nos adelantó que los dos grupos parlamentarios que apoyan al gobierno van a presentar una serie de enmiendas y según parece

para crear el ente público euskadiko kirol portuak que gestionará únicamente los puertos deportivos y de ocio

pero si en la misma enmienda admiten que les hemos dicho que desaparecerá kaiak

sí porque nos encontramos ante una incertidumbre desconocemos cómo se concreta el proyecto de gestión de nuestros puertos

y a partir de ahí hace una serie de preguntas y señala en un párrafo final que piensan que la mejor gestión es la directa de la administración

como si fuera una conversación de pasillo pero es que se les dijo formalmente por la consejera en una comisión se lo dijimos los grupos parlamentarios nacionalista y socialista en una comisión y le remitimos las enmiendas por correo como ya he dicho mucha desconfianza esto todo lo que hay primeras tres cuartas partes de la enmienda desconfiando que enmendemos nosotros la ley

y entonces alegando sobre ellas o la primera parte porque el texto era el mismo de hace un año o la segunda porque el texto renovado con las enmiendas no convence pero las dos

horrek bazuen konponbidea aukera izan duzue zuzenketen bidez hori konpontzeko y en su discurso de hoy lo mismo y lo único que hacen en la enmienda es una serie de preguntas que son gestionará la administración directamente los puertos de pesca y mercancía y un ente público los puertos deportivo y de ocio contestación sí lo dice las enmiendas de la ley segunda pregunta cómo se garantizará de ese modo la gestión integral de todos nuestros puertos contestación

del gestor del puerto pesquero y de mercancías y del deportivo es la misma institución y el mismo departamento y eso lo pone la ley y sus enmiendas y última pregunta

pues hombre esa pregunta quizás habría que haberla hecho el año dos mil que es cuando se creó euskal kirol portuak lo único que hace la ley

y transformarlo en un ente público lo que le confiere

y si hubiesen leído a fondo las enmiendas pues lo sabrían ya parece que básicamente les preocupa el modelo administrativo de gestión y en el anteproyecto de ley queda clarísimo los puertos se gestionarán en su generalidad por la propia administración y sus apartados de ocio también por la propia administración pero a través de un ente público llamado euskal kirol portuak por un lado y esto es porque por un lado

aspectos que esta ley las contempla con una serie de normas y reglamentaciones gestionados directamente por la administración pública vasca que es la titular de las mismas

se creó para gestionar directamente el servicio portuario en materia de puertos deportivos cuando esa actividad era todavía emergente escasa

de concesión a organismo privados y se decidió convertirlo en un servicio público

porque las exigencias y las características específicas de los servicios y operaciones portuarias en materia de puertos deportivos con un componente mucho más mercantil

y se asemejan mucho mas a una actividad comercial u hostelera que a una actividad puramente

requiere de una organización entendemos diferenciada de la administración

del servicio público del ferrocarril estas actividades comerciales a desarrollar en un puerto deportivo

no se crea ekp existe y se le da la característica de ente público

liquidación y recaudación de tasas y se le dota de instrumentos que mejoren su posición competitiva en un mercado emergente

y con una autonomía de gestión que un ente que ejercerá su actividad aunando criterios de servicio público con aquellos estrictamente empresariales

personalidad jurídica independiente especializada forma parte de la administración institucional porque su personalidad es solo una técnica organizativa

de los intereses generales de la administración la prestación de los servicios lo son en régimen de derecho público

por tales servicios dos cosas lo que viene a llamarse prestación patrimonial de carácter público precio y prestaciones de carácter público de naturaleza tributaria tasas y esto lo va a poder hacer al darle a través de esta ley el carácter de ente público gestionando parte del dominio público portuario

por el derecho administrativo en resumen la competencia en materia de puertos deportivos competencia exclusiva de la comunidad autónoma vasca la ejerce directamente la comunidad autónoma vasca titular política de la misma por medio de ekp

autónoma vasca en definitiva modelo de gestión previsto en la ley lo hay

la propuesta pero que la propuesta es clara no hay ninguna duda y desde luego sin apelar a enmiendas a la totalidad desde correcciones efectuadas con enmiendas parciales

ustedes podían haber propuesto su modelo alternativo de gestión para los puertos

el problema es que o bien no han leído las enmiendas presentadas por nuestro grupo y el socialistas vascos o bien han preferido ir directamente a una enmienda a la totalidad para no enredarse en la búsqueda de un modelo mejor que el que hayan podido observar en la ley aunque

es posible que ese modelo diferente no lo tengan en el fondo

es no aceptar que las enmiendas parciales que se han presentado modifican definitivamente la ley muchas gracias eskerrik asko tellería jauna

señora otamendi que desconocía la he visto demasiada enervada en otras cuestiones no suele usted

yo puedo entender que a ustedes les haya podido salir rana la jugada se lo respeto y entiendo que eso le incomode qué le vamos a hacer

fin usted vuelve a cargar las tintas ahora sobre

está absolutamente descartado bienvenida ya era hora podría haberse dado cuenta desde el mismo instante que le ha dicho el señor tellería que fue cuando

a través del propio señor tellería las enmiendas que ambos grupos íbamos a presentar que por cierto creo que fue un ejercicio no solo de responsabilidad sino de transparencia

y fuimos de cara desde un principio para que ustedes vieran que nosotros íbamos de cara íbamos de frente y que esa era la apuesta de los dos grupos que sostenemos al gobierno creo que eso no nos lo pueden ocultar creo que muy poquitas veces pasa

y fuimos de cara para que ustedes vieran realmente cuál era nuestra

yo sí le haría una pregunta porque luego ha cargado usted todas las tintas sobre

algún compareciente en la pasada legislatura solicitó la eliminación de ekp como sociedad anónima

no yo he repasado todas las comparecencias y en esas comparecencias la mayoría de los comparecientes decían que se tenía que mejorar el funcionamiento que podía ser más

alguno que lo puso en cuestión fíjese usted venía a darnos la razón a nosotros y solicitaba en algún momento que el régimen jurídico de esa sociedad

abajo en fin decía usted que nosotros éramos contrarios a crear nuevos entes que nuestro posicionamiento ha variado es que seguimos pensando

nosotros nunca nos hemos opuesto y en ningún momento hemos dicho que tenga que desaparecer nosotros hemos dicho que se tiene que variar de régimen jurídico estamos de acuerdo con el cambio de régimen jurídico

comporta entre otras cosas un mayor control de la propia administración sobre esa sociedad

que puede haber herramientas no solo de control sino de coordinación que permitan

y responda de manera mucho más rápida y mucho más eficiente a las solicitudes que por ejemplo se vengan a realizar desde los consejos municipales que por cierto también fue

a través de las enmiendas que hemos presentado no le veo mayor

yo creo que ese cambio de régimen no es la creación de un nuevo ente sino la mejora de un ente ya existente nosotros así lo entendemos y por eso lo apoyamos

no ha venido a cambiar es más creo que en muchos de los argumentos que ha puesto encima de la mesa ha venido a reforzar nuestra posición

y en anteriores proyectos de ley por tanto yo no le voy a discutir que la tramitación podía haber sido otra

es que esa tramitación hubiera vuelto al inicio y este gobierno hubiera presentado un nuevo proyecto de ley con todo lo que eso

también hubieran vuelto a poner palos en la rueda para intentar evidenciar que este gobierno

una ley más que necesaria pues mire se han dado con un canto en los dientes lo siento mucho les ha salido la jugada rana esta vez va a ser que sí esta vez va a ser que euskadi va a tener una ley de puertos

y que además la tramitación de las enmiendas va a ser espero y deseo que una tramitación

y que además creo a la vista del análisis que hemos podido hacer de todas las enmiendas presentadas que muy probablemente haya un amplio acuerdo y creo que debe de ser un motivo de satisfacción yo lamento que la jugada no les haya salido bien pero en este caso

adelante una ley que no solo los usuarios están reclamando sino que la propia administración la requiere para sí porque está en el ámbito de nuestras competencias y ya va siendo hora

el modelo de gestión lo he explicado suficientemente en las enmiendas y en la ley está explicado y yo me he leído sus enmiendas señora otamendi claro que me las he leído ustedes no tienen un modelo alternativo si hubieran tenido un modelo alternativo en la redacción de la enmienda a la totalidad la hubiesen hecho hoy no estoy discutiendo las enmiendas parciales

y la enmienda a la totalidad que ha enviado es una copia calcada de la que mandó hace dos años

no trasladan un modelo de hecho vuelvo a decir dicen desconocemos cómo se concreta el proyecto de gestión de nuestros puertos que tiene este gobierno lo dice

el modelo de gestión no es solo la forma jurídica

no es solo la forma ustedes vuelvo a insistir han trabajado con desconfianza con la desconfianza de que lo que les dijimos que íbamos a remitir enmiendas no lo íbamos a hacer y se lo dimos desde el minuto uno y por tanto

ustedes han trabajado con desconfianza en vez de confiar en ello y trabajar sobre las enmiendas que nosotros íbamos a remitir y ya una vez que ha renunciado a protestar tanto por kaiak visto que va a desaparecer retoma

desde el año dos mil y ahora se le da un carácter si cabe más público se lo he dicho y en la ley aparece más público todavía y creemos que el negocio de lo pesquero y lo comercial frente a lo deportivo son dos negocios diferenciados

modelos de gestión pública diferenciada otra cosa es cómo se haga con ese modelo público eso también aparece en la ley a eso nadie se mete solo se mete

nosotros vamos a insistir en que ese es el modelo ideal de partida de servicios públicos cómo se tienen que dar y luego veremos en los reglamentos en los decretos

también se lo digo podía haberlo pedido antes y no va a retrasar usted la ponencia porque ahora pida un informe al comité económico y social

no sé porqué insisten en que la ley de puertos tiene que existir pero al mismo tiempo intentan que no se apruebe pero la ponencia se tiene que conformar la semana que viene en cuanto tengamos una comisión empezaremos a trabajar y si el comité económico y social

muchas gracias señora presidenta señor tellería reconocerá usted que el trámite

y en aras a ver si llegamos a un acuerdo evidentemente nos hemos abstenido

y al mismo texto las mismas enmiendas y usted comprenderá que nosotros no podíamos enmendar las enmiendas que ustedes iban a plantear ahora bien

pero nosotros sí tenemos que decir una cosa nosotros sí echamos en sus enmiendas

se modifica la contabilidad se modifican los balances se modifican los presupuestos ustedes plantean que ekp controle o gestione todo los puertos vascos

cosa que hoy no hace cosa que hoy no hace y hoy no ocurre en todos los puertos vascos y en fin

y no puedan ser los usuarios de esos puertos y lo que nos tendrán que convencer también porque en esta

desde luego el grupo popular lo que va a defender son los intereses de los usuarios y si este planteamiento que ustedes nos están haciendo

va a suponer un sobrecosto y ese sobrecosto se va a trasladar a los usuarios y estas cosas nosotros se las vamos a plantear a ustedes en la ponencia y espero que lleguemos a un acuerdo que beneficie a los usuarios de los puertos deportivos porque el resto queda igual y aquí

y permítame recordarles que nosotros vamos a defender a los usuarios de los puertos deportivos y por cierto la sede está en vitoria

porque cuando se creó inicialmente que solo gestionaba el puerto

eta kasu horietan kontrol publikoa funtsezkoa da eta kolokan geratuko da voy a leer sin más un párrafo en la exposición de motivos de la propia ley

y todo ello con la garantía la transparencia y el rigor en el control que solo la administración pública puede garantizar se dice esto en la exposición de motivos y luego

una ley y se va a aprobar rápido yo creo que señor andueza cuando usted habla sube el pescado nunca mejor dicho
le tomamos la palabra porque me da la sensación de que nos vamos a ver en esta ponencia bastante más de lo que usted quiere gracias eskerrik asko becerra jauna gai zerrendako bigarren puntua

buenos días gracias señora presidenta señores consejeros señora consejera

alegación referente al convenio de colaboración entre la administración general de la comunidad autónoma vasca la diputación foral de álava y el ayuntamiento de vitoria a fin de promover la financiación conjunta y la realización de diversas actuaciones de su competencia necesarias para la implantación de la electrificación en el transporte público urbano

de un sistema de bus eléctrico inteligente en la actual línea dos periférica de la ciudad a este convenio le precede uno anterior de junio de dos mil dieciséis entre las mismas administraciones donde se comprometen

sostenible en vitoria y su apuesta por incidir en la electrificación del transporte público y en la definición de un carril reservado que optimice los tiempos de viaje convenio junio de dos mil dieciséis como les decía

para adecuar la oferta de transporte público en la ciudad de vitoria gasteiz en este contexto el convenio que hoy nos ocupa contempla la financiación del proyecto

en vitoria previo a las cláusulas del convenio se expone

amplia la capacidad legal para celebrar este convenio de colaboración de cada una de las administraciones que suscriben este convenio se hace referencia a la ley orgánica

de autonomía del país vasco competencia en materia de ferrocarriles transporte terrestre marítimos fluviales del país vasco helipuertos puertos y por cable sin perjuicio de lo que dispone el artículo ciento cuarenta y nueve de la constitución el punto uno

donde se hace referencia a los transportes marítimos transportes terrestres de interés general también se hace

y tranvías del país vasco que también se refleja en la ley de territorios históricos ley en la que se dice también las competencias de la diputación foral

también se hace referencia a la ley de territorios históricos

alta inspección planificación y coordinación en materia de transportes mecánicos por carretera el ayuntamiento de vitoria como competente en materia de transporte colectivo de viajeros en el artículo

en la ley de bases del régimen local que establece que el transporte colectivo urbano de vitoria como servicio mínimo obligatorio para municipios de más de cincuenta mil habitantes

de instituciones locales de euskadi que establece las competencias de los municipios entre otras ordenación gestión ejecución

ordenación planificación programación gestión disciplina y promoción de los servicios urbanos de transporte público de personas cualquier tipo de transporte que se use dentro de sus términos municipales señorías la mitad del texto

es todo un glosario de leyes que de una u otra manera hacen referencia a competencias de la administración general de la comunidad autónoma vasca en temas de transporte

para concluir que son las instituciones locales el ayuntamiento de vitoria en este caso el único competente en ordenación planificación programación gestión disciplina

pero el gobierno ha impulsado este proyecto y a nosotros nos alaga porque desde esa supuesta labor ejemplarizante en la reducción de las emisiones de gei

emite nos parece ejemplarizante como decía que participe en este proyecto y además

dado el carácter transversal del transporte hay que tener muy en cuenta

del plan director de transporte sostenible de euskadi dos mil treinta

e integrado como instrumento de cohesión social y de desarrollo socio económico de euskadi y a través del mismo el gobierno se compromete a formular una política común en materia de transporte en euskadi para los próximos años

en materia de reducción de emisiones de gases efecto invernadero así la estrategia que se aprobó en esta cámara también de cambio climático dos mil cincuenta

de ruta para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y alzarnos al cambio climático y también la estrategia energética de euskadi dos mil treinta impulsa el cambio hacia un nuevo modelo de consumo energético incorporación progresiva de las energías renovables y la energía eléctrica como principal objetivo

en la agenda dos mil treinta muy importante interiorizar este compromiso y donde se hace hincapié en las ciudades sostenibles entendiendo la sostenibilidad desde

el aspecto medioambiental pero también desde el aspecto social y el aspecto económico

participa en este proyecto no porque sea competente participa en este proyecto porque el ayuntamiento de vitoria no tiene dinero para afrontar

que espero que sean para todo euskadi y para todas las ciudades de euskadi porque la batalla de la sostenibilidad se ganará o se perderá en las ciudades en los núcleos urbanos y por lo tanto ese compromiso que el gobierno muestra con la ciudad de vitoria

con las demás ciudades del país vasco y los núcleos urbanos por esto

iniciativas que avancen hacia la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y como en este caso el gobierno vasco junto con la diputación foral de álava

mediante el bus eléctrico inteligente y es en este convenio de financiación donde se compromete

pero sorprendentemente en este caso este convenio falta una parte importante del proyecto que es el elemento básico

que se pueda desarrollar con normalidad este proyecto que son las cocheras se expuso en la interpelación que el señor becerra planteó a la señora consejera

y sorprendentemente uno se pregunta cómo es posible que estemos hablando de dar un mayor protagonismo a la movilidad eléctrica mediante la puesta en marcha de una experiencia innovadora para resolver la

y nos dé igual en qué condiciones se guarden las trece unidades que supone esta nueva implantación del bei que tienen entre doce y dieciocho metros nos dé igual dónde y en qué condiciones o se ubiquen dónde se va a ubicar la instalación de baterías que permitan recargar estos vehículos resulta señorías que la parte innovadora estratégica de este proyecto que son

de vehículos que compramos y la instalación de baterías se quedan fuera de la financiación

ni de una experiencia innovadora estamos hablando de qué de comprar unos autobuses sí el proyecto se ha quedado

y qué dijo la señora consejera aquí que lo demás es competencia municipal oiga pero en qué quedamos

tenemos compromiso con experiencias innovadoras que reduzcan las emisiones de gases

o no tenemos compromiso o no o solo un poquito de compromiso

interesante muy interesante yo quiero decir dónde está la ejemplaridad de la administración en este caso dónde está se ha quedado fuera del proyecto la ejemplaridad el proyecto se acaba en la compra de las unidades

que en el convenio previo cuando deciden iniciar los proyectos no se pone encima de la mesa dónde vamos a ubicar la parte eléctrica de esto que es

más las trece unidades que ocupan un espacio importante

me comprometo o no me comprometo ah no tengo competencias sí tengo competencia porque me quiero comprometer

señorías creo que requiere que este proyecto se aborde en su conjunto

nosotros que estamos de acuerdo con convenio pero lo que queremos es que sea un convenio completo

el grupo popular fue un acuerdo que se aprobó en el ayuntamiento de vitoria el día veintiséis en el pleno donde se instaba al ayuntamiento a que se aborde en su conjunto y que en el convenio también se contemplen las fechas

por la administración pero señorías nosotros hemos presentado esta alegación porque lo acordó

en pleno y porque consideramos imprescindible y porque además no solo lo dice el grupo popular en esta cámara o en el ayuntamiento

o de algún otro que tiene transformación en estos metros que hay entre el ayuntamiento y el parlamento

los técnicos de tuvisa que creo que algo saben de esto ya han manifestado públicamente diciendo que este proyecto no tiene sentido

la ubicación las nuevas cocheras por lo tanto señorías nosotros presentamos esta alegación también vamos a votar a favor

la moción que ha presentado podemos compartimos plenamente la exposición de la interpelación y la moción por lo tanto esa va a ser nuestra posición

ante este convenio y ante la moción vamos a oír lo que dicen los demás grupos y

incidiremos más en nuestro criterio eskerrik asko

pero sí tengo que decir que como ciudadano me quedo de piedra viendo cómo en un caso como el de las cocheras de vitoria ante una necesidad real

sin que nadie le hinque el diente a la cuestión sin que nadie se preocupe de cuáles son las

porque aquí hay un problema que pusimos de manifiesto nuestro grupo primero en el ayuntamiento y luego aquí y es que vitoria necesita unas cocheras de autobuses nuevas esta necesidad

obsoletas y el brt cuenta con una serie de necesidades técnicas muy concretas a las que debemos responder necesitan más espacio

esto lo dijo el alcalde cuatro meses antes todos los grupos excepto el partido popular

sometieron a votación el mostrar preferencia a la ubicación de la infraestructura de la sociedad en la parcela del vivero municipal estoy refiriéndome a las cocheras

la abstención del partido popular aquí tengo el acta de la reunión todos los grupos manifestaron que estas cocheras eran

necesarias y cuando se pone eso de manifiesto en el ayuntamiento a través de una moción del grupo

hay una mayoría del pleno que se pronuncia a favor

se necesitan las cocheras y de que el proyecto del bus eléctrico inteligente debe incluir esas cocheras en el convenio para que sea un proyecto completo para que no

hasta aquí las necesidades efectivamente dijimos que se iba a poner en marcha una infraestructura nueva la del bus inteligente pero los autobuses nuevos

unas cocheras necesitan unas cocheras y la solución que se dio

que ese proyecto de cocheras se incluyera dentro del proyecto del bus eléctrico inteligente porque solo esa es la solución buena cualquier otra solución

o cualquier otra que se busque son remiendos son parches y son

bien nuestro grupo aquí en el parlamento una vez que supo de la decisión mayoritaria del pleno interpeló a la consejera no con la intención de meterle el dedo en el ojo sino con la que diera una solución porque en ese convenio que ahora ha denunciado el partido popular

y le dejamos claro a la consejera también antes de hacer la interpelación que estábamos dispuestos a no meter una moción siempre y cuando el gobierno diera una respuesta satisfactoria

metimos la moción una moción coherente con la que se había aprobado en el ayuntamiento exactamente palabra por palabra la misma moción que se había aprobado en el ayuntamiento

viene dada por tres pilares uno como ya he dicho las cocheras son necesarias dos

y tres no nos importa cuál sea el instrumento que utilice el gobierno para meterlas en el convenio pero tienen que estar

en mi primera interpelación que en esta cuestión yo veía muchos intereses por correr muchos intereses por hacer las cosas con prisas y mal muchos intereses por cortar la cinta y hacer inauguraciones antes de tiempo y muy poco interés por defender las necesidades de la ciudad y por defender las necesidades
de la ciudadanía de vitoria gasteiz espero equivocarme pero creo por desgracia que no es así muchas gracias eskerrik asko

lejos de criticar esta cuestión creo que debemos de poner en valor el convenio firmado entre instituciones y además creo que tenemos muchos argumentos

abordaré y creo que es muy destacable y muy factible el hecho de poner en valor

interinstitucional eso para empezar que no siempre suele ser fácil y no siempre suele ser factible y en este caso creo

va a suponer la puesta en marcha de un proyecto que indudablemente tiene unos componentes en cuanto al favorecimiento de la movilidad sostenible de la eficacia de la eficiencia

que va a mejorar sustancialmente la movilidad en vitoria gasteiz que puede ser un ejemplo exportable

en marcha en otras capitales de euskadi como por ejemplo donosti creo que es una experiencia innovadora en cuanto a la apuesta por la movilidad eléctrica

apuesta del gobierno vasco de la propia diputación foral y por supuesto como no podía ser de otra manera del propio ayuntamiento de vitoria gasteiz hacia la propia ciudad

en valor y creo que es un proyecto que además favorece otras cuestiones como la recuperación de espacios públicos como

en la comunicación de zonas urbanas de vitoria gasteiz que no tenían una buena comunicación como le decía anteriormente por la sostenibilidad por el uso del transporte público frente al vehículo privado en fin creo que este tiene bastantes más beneficios que perjuicios o yo cuando menos únicamente le veo beneficios en eso creo que todos deberíamos de estar de acuerdo creo que estamos todos de acuerdo porque después de algunas intervenciones no sé

ocariz que el ayuntamiento es competente en esta materia usted lo ha puesto en duda y yo no tengo ninguna duda en tanto en cuanto estamos hablando de transporte

y los ayuntamientos tienen plena competencia en esta cuestión tienen plena competencia en esta cuestión y creo que un hecho que así lo demuestra es que

incluso sin estar presentes en autoridades del transporte y asumiendo en exclusividad esa competencia

que son competentes en esta cuestión ustedes nos han dicho que nos da igual dónde se guarden esos autobuses no eso es faltar a la verdad

nosotros en ningún momento hemos dicho que nos dé igual que hay compromiso

si este gobierno va a asumir el sesenta y cinco por ciento de los cuarenta y dos millónes cuarenta y dos millónes que cuesta este proyecto

si va a asumir el sesenta y cinco por ciento del coste total que no es mínimo que son cuarenta y dos millónes acaso le parece poco compromiso acaso le parece poco compromiso pues yo creo que es un compromiso más que suficiente y no no nos preocupamos única y exclusivamente

no porque este convenio así lo pone de manifiesto nos preocupamos del desarrollo del proyecto de la puesta en marcha de un proyecto absolutamente

de ese proyecto sino al propio hecho de innovar de desarrollar un proyecto que como le decía antes puede ser perfectamente exportable que también

para las empresas del sector que van a trabajar en este proyecto porque también supone cambios urbanísticos porque supone la recuperación de nuevos espacios urbanos porque supone una mejora sustancial en la movilidad de los

porque supone una apuesta clara por la sostenibilidad le parece poco compromiso le parece que eso se limita única y exclusivamente a la compra de unas unidades

en cualquier caso que ustedes única y exclusivamente resuman todo este convenio en la compra de esas unidades pone de manifiesto

su poca visión al respecto de este proyecto pero claro no me sorprende no me sorprende porque observando cuál fue la gestión de su alcalde o de sus alcaldías

en esta ciudad pues me deja muy a las claras verdaderamente cuál es su compromiso

en vitoria gasteiz sino a nivel general por tanto en fin pues deje que ponga en duda muchas de las cuestiones o de las preguntas que ha puesto usted aquí encima de la mesa yo pongo en duda que técnicamente sea necesaria la construcción de unas nuevas cocheras

única y exclusivamente con adecuar las existentes probablemente pudiera bastar pudiera bastar habrá informes técnicos que así lo avalan y lo dirán y estoy convencido que lo van a decir qué quiere que le diga en fin

que en este sentido pueden adecuarse no va a haber problemas técnicos y ese proyecto va a salir adelante muy a pesar de ustedes que probablemente lo que quieran es que ese proyecto no salga adelante pues bueno pues mala suerte decía el señor becerra que

porque son ustedes la píldora de la solución o

si por su llegada a la política no fuera de verdad le digo que no sé qué hubiera sido de nosotros se lo digo de verdad no sé qué hubiera sido de nosotros

pero créame que este país ha funcionado muchos años y muy bien sin estar ustedes presentes por tanto bueno sí señora arana se lo puedo asegurar no sé como se ha reído

con diferentes gobiernos con diferentes oposiciones también y va a salir adelante a pesar de que ustedes no estaban

ustedes no estaban y este proyecto ya se estaba elaborando que se necesitan cocheras insisten yo digo que

me sorprende que ustedes que siempre son tan partidarios de optimizar recursos pongan todos los huevos en la cesta de desarrollar un proyecto como es la construcción de las nuevas cocheras sin tan siquiera conocer

de adecuar esas cocheras para poder albergar esas unidades que se van a comprar o que se tienen que adquirir a mí me gustaría que ustedes fueran más prudentes y por lo menos nos dieran el beneficio de la duda antes de meterse en un proyecto tan importante o en un coste tan importante con lo que eso puede suponer

el desarrollo de cualquier proyecto usted ha hablado o ha dicho que el gobierno no ha dado una respuesta satisfactoria a esta cuestión

que le corrija porque es que el hecho de que el gobierno no haya dado la respuesta que ustedes querían no quiere decir

pero es que muchas veces tienen la costumbre de mezclar unas cosas con otras y cuando el gobierno no da la respuesta que ustedes quieren dicen que el gobierno no ha dado la respuesta adecuada bueno eso está por ver

me sorprende una cosa que siendo los dos grupos proponentes dos grupos tan sumamente implicados en este proyecto que les preocupa tanto este proyecto y que tantos desvelos les causa sobre todo en el tema de la construcción

me sorprende que teniendo tanta preocupación ninguno de los dos grupos hayan sido capaces de incorporar o de proponer una enmienda a los presupuestos de este gobierno

ya hay un informe de marzo del dos mil quince que habla de la necesidad de nuevas instalaciones además sobre todo para contemplar los requerimientos que necesiten los vehículos nuevos le puedo enseñar luego también las actas de diferentes consejos de tuvisa y creo que aquí igual la correa de transmisión de la información no ha sido la adecuada porque desde luego en los consejos de dos mil dieciséis del catorce

la propia presidenta de tuvisa que es teniente de alcalde lleva al consejo la necesidad de estas futuras cocheras en octubre de dos mil dieciséis tal y como

además con la frase que él ha dicho en noviembre de dos mil dieciséis vuelve a ser también el pnv el que habla de nuevas cocheras la necesidad con capacidad para ciento cincuenta autobuses de los cuales reserva

y vuelve a ser también en febrero del año pasado una vez que hemos acordado la nueva financiación donde otra vez

que el proyecto también va a abordar el punto de las nuevas cocheras de tuvisa

euskal herria bildu traemos hoy aquí una propuesta que pretende desbloquear este punto en el que está el proyecto y desde luego la interpelación es evidentemente hacia el gobierno fundamentalmente hacia el partido nacionalista vasco porque la verdad es que nos encontramos hoy aquí por la actuación del alcalde de la ciudad

que él ha generado porque en su momento decía la señora tapia que esto debe resolverse en el ayuntamiento y creemos que tiene razón tiene razón pero si en el ayuntamiento el alcalde opta por la política del avestruz y por no hacer frente a los problemas pues la perjudicada siempre va a ser la ciudadanía

porque no podemos permitir que la gran pagana sea la ciudadanía y euskal herria bildu les está poniendo sobre la mesa una posibilidad de desbloquear esta situación porque desde luego el azkarbus es un proyecto bueno no es un proyecto muy bueno

también tienen efectos negativos y este proyecto también los tiene y entre otros

este proyecto también viene a cargar aún más una rotonda ya sobrecargada que vamos a hacer que todavía se cierre más ese cuello de botella a la entrada de la ciudad por el norte este proyecto también va a suponer una prueba a una sobrecargada ronda sur

y eso significa mejorar el proyecto enriquecerlo porque los problemas no desaparecen por negarlos al contrario se hacen aún mayores normalmente por eso

es bastante sorprendente que se niegue la necesidad de cocheras porque se faltaba a la verdad en dos mil dieciséis o se falta a la verdad ahora y eso es lo que es poco entendible desde luego euskal herria bildu les propone

no fomentemos la frivolidad se pueden arreglar las cosas ahora bien y si no lo tendremos que hacer tarde y mal y eso nunca es deseable desde luego creemos que hay que demostrar responsabilidad y eso es lo que nos pide tanto el momento

estas responsabilidades luego también nos lleva a decir que no al escrito de oposición que presenta el partido popular han dicho no en esta tribuna pero sí públicamente que este escrito haría vinculante al gobierno incorporar las cocheras pero no es así

y voy a reconocer aquí como dijo la consejera en su momento que este es un proyecto desde luego

de apuntar habría que apuntar lo contrario bueno yo no vengo a reprochar en estos momentos nada vengo a desbloquear desde luego euskal herria bildu no va a estar en la paralización del proyecto

acometer todo lo que hace falta pero sin paralizarlo aunque tampoco sabemos si esto va a ocurrir sabemos que es posible no que vaya a ocurrir efectivamente vamos a intentar y esa es la pregunta que dejamos al gobierno si va a estar por arreglar todo lo demás o si no vamos a tratar de impulsar este proyecto sin retraso y desde luego acometiendo todas las cuestiones porque repito es que se puede hacer ahora o lo vamos a hacer tarde y mal señora lópez de ocariz por rigurosidad el sistema de baterías que dice usted que no está está incluido está en la página cincuenta y uno del informe está pero bueno también

bueno no ha comentado pero en el propio informe también se habla de las cocheras tiene razón en eso

en el plano que presentan como desde luego en la página que hace referencia a la descripción de las comunicaciones donde se habla

eso también tiene toda la razón y no entendemos nadie por qué ha caído esta es una de las cuestiones que creo que son importantes decir señor becerra

una pequeña cuestión cuando usted dice que la moción que ha traído es la misma que se aprobó en el ayuntamiento no es cierto no es cierto

que lo que ha incorporado estábamos de acuerdo pero se le ha olvidado a usted en el texto aprobado hay un cuarto punto digo el tercero bueno el tercero era que se presente y se traslade el acuerdo no les estoy haciendo referencia a eso pero el cuarto decía y además es algo que

entre ustedes entre también el partido popular que dice lo siguiente el pleno del ayuntamiento de vitoria gasteiz insta al gobierno municipal a que con anterioridad a la licitación del proyecto del azkar bus

en el que especificará fecha de presentación del proyecto fecha de licitación de las obras y periodo constructivo igualmente le insta

de este medio de transporte o que afecten negativamente a los vecinos y vecinas de vitoria gasteiz y lo metimos porque nos parece importante porque creemos que las cocheras son importantes pero creemos que se puede hacer en paralelo y sin retrasar el proyecto eso es lo que planteamos constantemente le damos importancia a esta cuestión como le damos

no ve pero cuestiones que van a afectar directamente a los y las gasteiztarras como va a ser también américa latina y rondas

pero que hay una parte que es cierta no se han trabajado lo suficiente y eso es una responsabilidad que no ha acometido el gobierno municipal

lo demanda lo necesita y además que hay que hacerlo de esa manera si al menos se cree en seriedad en la forma de llevar adelante los problemas pero también creemos

es una parte que nos parecía importante antes y nos sigue pareciendo importante ahora

creo que es muy importante impulsar el proyecto pero la política del avestruz de negar los problemas tampoco ayuda

hay una parte que parece que esté haciendo eso y creemos que no ayuda es mejor

poner los cronogramas sobre la mesa no incidir no retrasar

pero negar la realidad nunca ha conseguido que desaparezca eskerrik asko

egun on egun on berriro berriro berriro hoy estamos aquí en un debate municipal porque especialmente el partido popular

buscar cualquier recoveco administrativo cualquier foro para traer sus cuitas su ojeriza

para hablar donde no corresponde y para una vez más intentar bloquear cualquier proyecto de desarrollo de la ciudad de gasteiz

vamos a la historia la propuesta de autobús exclusivamente eléctrico es una propuesta del gobierno vasco sí al ayuntamiento de gasteiz en dos mil quince

para trabajar sobre un transporte no contaminante con prioridad en su recorrido se vieron otros modelos en otras ciudades y se decidió avanzar en la implantación del mismo por lo que yo sé

grupos a los que realmente les compete analizar y debatir la necesidad de este proyecto en ese proyecto se incluyó la colaboración con la diputación foral de álava y se materializó en dos convenios de colaboración de las tres instituciones el primero

para estudiar soluciones problemas que se pudieran ocasionar con la implantación del nuevo bus eléctrico

ese convenio se envió a este parlamento en mayo del dos mil dieciséis y aquí se aprobó implícitamente porque se pasó olímpicamente de él

y el proyecto concreto los cuales se han transferido al ayuntamiento que es el espacio administrativo al que le corresponde licitar las diferentes fases que permitan poner ese autobús en marcha

corresponde licitarlo y para ello hace falta disponer de presupuesto de chines

esta es la breve historia del acuerdo y su recorrido desde que la idea surge y hasta que se va plasmando de una manera conveniada entre administraciones

o implícitamente por todos los grupos que pueblan este parlamento porque todo se plasmó con números en los presupuestos de la diputación foral de álava y del gobierno vasco

se aprobó la partida del presupuesto del gobierno vasco dos mil dieciocho número

llamada convenio con ayuntamiento de vitoria bus eléctrico

y un crédito de compromiso para dos mil diecinueve de diecisiete coma cuarenta y seis millónes de euros fue aprobada con el apoyo explícito del partido popular y sin que en el trámite de enmiendas parciales

el veintidós de diciembre del dos mil diecisiete ni dos meses han pasado

pp elkarrekin podemos como eh bildu enmendaron de esa dirección de infraestructura de transporte un montón de partidas concretas que no sé qué parking de leioa que si el tranvía en zabalgana

pero la partida para la línea dos del autobús eléctrico de circunvalación en gasteiz

el presupuesto global ni los que lo rechazaron de lo que deduzco era una partida que el cien por ciento de este parlamento aceptó le parecía lógica

debemos de aflorar un poquito nuestra personalidad estaban de acuerdo en avanzar con este proyecto hasta que una vez que cogió velocidad de crucero que elkarrekin podemos interpelaba al gobierno pues aparece el partido popular

como un partido incapaz de digerir que se encuentra en la oposición incapaz de aceptar que alguien que no sean ellos pueda finalizar un proyecto por pequeño que sea y denuncian el convenio aprovechando un hueco reglamentario porque si el convenio estuviera firmado exclusivamente con el ayuntamiento beneficiario último del proyecto

el convenio se firmó a tres para visualizar más claramente la colaboración interinstitucional resultando que el partido popular ha encontrado en esa posición de transparencia

para pedir paralizar un proyecto que la ciudadanía de gasteiz espera que euskadi espera para comenzar a avanzar por la senda de la movilidad sostenible del desarrollo de nuevos vehículos

y en definitiva que todos esperamos para avanzar como país pero no en su acantonamiento en el ayuntamiento de gasteiz y a falta de una plataforma o plataformilla en la que basar su oposición

bloqueando el procedimiento administrativo que permita financiar un proyecto ya elaborado con un convenio previo que no se les ocurrió denunciar porque estaban de acuerdo con él

les da igual apostar por el tranvía cuando ustedes gobiernan que denostarlo e intentar

aprobar implícitamente el convenio para la redacción de un proyecto concreto y aprobar su presupuesto que posteriormente y cuando ya se va a comenzar a ejecutar el mismo bloquearlo la cuestión

es no querer que gorka urtaran haga un proyecto mientras ustedes no estén en la alcaldía

y tensionar permanentemente a la sociedad vitoriana puede ocurrir que sin denunciar el convenio

y sumando apoyos al partido popular para pretender el bloqueo bueno serían los mariachis del partido popular

es cierto que es diferente la moción que presenta elkarrekin podemos y que se diferencia de la denuncia del convenio en su actitud propositiva y de no bloquear la puesta en marcha del bei la entendemos parcialmente incluso hemos intentado transaccionar por entender que algo podríamos pactar aunque insisto es un asunto puramente

municipal desde el momento en que se trata de un proyecto con un primer convenio aceptado por todos con un presupuesto ya aprobado por todos y que nunca contempló unas cocheras y que pudiera que no sean necesarias en este momento pues no parecería normal solicitarlas desde un parlamento para que un gobierno pague una materia de la que no es competente porque grupos municipales se pongan de acuerdo

para intentar dañar la imagen de un alcalde una cosa es ponerse de acuerdo con una moción y otra cosa es como alternativa a no ponerse de acuerdo bloquear

yo aquí vine para hacer política parlamentaria no para dirimir conflictos municipales que eso lo hago en otro sitio y a otras horas y en este caso ni eso esto es bloquear un convenio entre el gobierno dispuesto a financiar un proyecto de autobuses municipales y un ayuntamiento

y nosotros tenemos informaciones de que no lo son si inicialmente no estaban previstas y nadie dijo nada si hace dos meses aprobamos todos unos presupuestos que no incluían tales cocheras y nadie dijo nada a qué viene que ahora que nos empeñemos en sin más hacerlas necesarias

resulte que vendría bien modernizarlas o hacer unas nuevas que pudiera ocurrir entonces el gobierno

una adenda al convenio para cooperar en su puesta en marcha que puede ser de mil formas que hay maneras desde la elaboración del proyecto hasta la financiación completa pero siempre considerando que es una materia municipal y que euskadi tiene que yo sepa por lo menos doscientos cuarenta y ocho municipios el debate municipal

donde priva una especie de lucha preparatoria para las próximas municipales dejando de lado sacar proyectos de ciudad para si es menester bloquearlos

de que los grupos municipales disfruten de sus peleas en el barro aquí nadie ha obligado a nadie hoy los grupos parlamentarios debatimos sobre el asunto municipal

y que por la obsesión del pp con el alcalde legítimo gorka urtaran

de volver a bloquear un proyecto de los de seguir construyendo ciudad pareciendo que si no son ellos los que lo hacen

una ciudad que exclusivamente ellos deben construir en fin este debate que insisto nunca debió salir del ámbito del ayuntamiento de gasteiz me gustaría que finalizara hoy aquí pero conociendo como se comporta el pp en el ayuntamiento

señor andueza no escucha qué le vamos a decir y luego

porque traía ya pensado lo que iba a decir no escucha

es muy difícil pero tampoco ha hecho ningún esfuerzo por conocerla ni estudiarla por lo tanto

que ha sido bastante complicada me hablan de los presupuestos también el señor tellería que utiliza

como terapia en vez de ir a la consulta médica correspondiente señor tellería los presupuestos

el consejo de gobierno este convenio a finales de diciembre

pedimos el proyecto al gobierno y no lo mandaron

las iniciativas de esta parlamentaria y de este grupo

vean el histórico y el trabajo que hacemos

no trabajada no contrastada porque no tienen argumentos este acuerdo de convenio como le decía es de finales de diciembre

municipal es competencia municipal y es el ayuntamiento

de poner en marcha el transporte señor andueza yo he dicho aquí que el único competente es el ayuntamiento

yo ya entiendo que es muy que no le interesa lo que yo diga pero no

nos encargamos de la colaboración en la implantación decía la señora consejera no es competente pero se encarga de la colaboración en la implantación

señoría estamos hablando de un proyecto que su parte estratégica es una incógnita sí contempla la parte eléctrica

que mañana hay que moverlas esa provisionalidad

nosotros no porque entendemos que hay que abordar el proyecto en su conjunto y se nos negó la información de conocer el proyecto que estaba

en esta cámara y mírense las respuestas mírense lo tenía que aprobar la comisión competente que tampoco decían qué comisión para poder trasladarlo esa es la transparencia con la que hemos trabajado

en el ayuntamiento y tampoco se ha dado la transparencia a este grupo señor tellería sí a este grupo

estos mariachis que le aprobamos los presupuestos mire le pido respeto y segundo le pido que retire la palabra

mariachi será usted les decía que es un proyecto que le denominan estratégico y la carga eléctrica no sabemos dónde se va a colocar con lo cual

entendemos que esto es una provisionalidad que no se admitiría la iniciativa privada porque ahora vendrán colocaciones de cargas eléctricas solicitadas por empresas privadas

ya veremos en qué condiciones van a poder instalarlas ya sacaremos un reglamento para el privado la administración últimamente de ejemplarizando tiene poco lo hemos visto en el tranvía sur que empiezo hago la licitación saco concurso empiezo las obras y empiezo a modificarlo

se la admitimos a la iniciativa privada no

lo que nos da la gana como nos da la gana transmitimos la información

desde el gobierno vasco la señora consejera dice que nunca se ha hablado de las cocheras pues señorías me parece una irresponsabilidad que nunca hayan tenido

no le preocupó es incomprensible tal chapuza

y luego para nota el señor alcalde el viernes

el viernes que rechaza cualquier ayuda económica señor tellería que dice que luego una adenda del convenio que lo ha rechazado el señor alcalde que no quiere

y luego ya para cerrar el arco viene el abrazo del oso de

es hundir los proyectos de vitoria hundir hacer chapuzas me da igual el tranvía sur que este chapuzas pudiendo haber sido dos proyectos bien proyectados y con sentido común y con el consenso de la ciudadanía dos proyectos que son dos chapuzas

y la señora larrion y eso es lo que tenemos en este momento ya veremos cómo va amaitu mesedez pero desde luego un proyecto estratégico provisional

impulsado por la administración esto no se consentiría a la iniciativa privada

es un asunto municipal sabe que nada de lo que afecta a la capital de euskadi por desgracia es un asunto municipal

nada y por eso vienen aquí viene aquí eso y viene aquí muchas otras cosas ya se lo ha dicho la señora lópez de ocariz pero si no se enmendaron los presupuestos fue porque

al autobús eléctrico inteligente lo que no conocíamos era el contenido del convenio cuando se conoce el contenido del convenio obviamente y se ve que no están las cocheras pues claro se actúa en consecuencia desde el ayuntamiento desde el ayuntamiento no lo trajimos primero al parlamento primero se llevó al ayuntamiento

nuestro grupo es favorable al proyecto y que también somos contrarios a paralizarlo señora larrion claro que sí por supuesto y a evitar los decalajes negativos a los que se refiere nos gustaría que no sucediera y por eso nos hemos

utilizar para evitar esos retrasos y para garantizar

pero quién ha estropeado este acuerdo el señor urtaran el señor urtaran es el que ha estropeado este acuerdo el señor urtaran el viernes lo dinamitó diciendo

para construir las cocheras diga que no le hace falta el dinero del gobierno

increíble increíble y usted no ha hecho ningún favor señora larrion ayer diciendo que bueno que puede llegarse a una solución intermedia pagando menos el gobierno desde luego a la ciudadanía de gasteiz no creo que le haya hecho ninguna gracia

encima usted diga que todavía van a pagar más y que le perdona parte del dinero al gobierno no tiene ningún sentido tengo que decirle que si ustedes finalmente no votan a favor de esta enmienda a la totalidad no solamente van a tener un voto incoherente con lo que sí votaron en el ayuntamiento sino que van a conseguir tres cosas

la segunda que el día que las quieran construir se las van a pagar todas de su bolsillo y la tercera que este bus

nazca cojo desde el principio eso es lo que se va a conseguir y me gustaría que lo reconsideraran pero como digo no es usted la principal responsable ni le voy a hacer el principal responsable de esta cuestión es el señor urtaran y yo le diría al partido nacionalista vasco si de cara a las elecciones municipales del año que viene no tiene un mejor candidato que sospecho que no lo tienen pues que igual se planteen la posibilidad de que la candidatura sea

eskerrik asko mahaiburu anderea pues si quieren que le sea sincero no sé por dónde empezar porque me ha parecido que sobre todo este tramo final del debate ha sido de muy mal gusto

pero me parece que ha sido una absoluta falta de respeto por su parte señor becerra y a usted que muchas veces le molesta tanto que le toquen los costados si le molesta tanto procure no hacer lo mismo con los demás

señora lópez de ocariz dice usted que me pilla muy lejos la realidad de vitoria de eibar mire

que tengo muchos emisarios en vitoria entre otras cosas porque los eibarreses allá por los años setenta repoblamos esta ciudad en

en aquella época a vitoria así que bueno no le voy a decir que medio vitoria es de eibar aunque pudiera decirlo ha dicho que no le he oído

y eso hay muchas veces que me permite que mi sentido auditivo pues quizás sea más agudo de lo que

que en sus palabras he atisbado que usted quería poner de manifiesto o quería excluir de responsabilidad al ayuntamiento cuando estábamos hablando

en el que permita que le diga es pleno competente y lo que pasa que muchas veces estamos acostumbrados a que mamá administración o papá administración pues bueno

pero en cualquier caso mire para saber que el ayuntamiento tiene plena competencia en materia de movilidad

de gobierno en el ayuntamiento de vitoria poco no por no decir nada porque no movieron ni un cuarto de línea de autobús cuando ustedes gobernaban vitoria ni un cuarto de línea de autobús porque no se preocuparon absolutamente de nada así que ahora no venga a hacerse la víctima aquí

ustedes no movieron un dedo y muchos de los proyectos que sacaron adelante

venían de la legislatura anterior si la inacción

cuando no movieron un dedo en fin que ustedes no soportan que otros partidos gobiernen en el ayuntamiento de vitoria se lo admito mire

mucho trabajo pero trabajo de verdad del proactivo trabajo positivo para sacar adelante los proyectos no para entorpecer los proyectos que otros quieren poner en marcha

decía el señor becerra que no conocían el convenio y me sorprende ustedes que todo lo conocen que no conozcan ese convenio que era público poco menos que me sorprende ustedes dicen que apuestan por este proyecto le repito y le reitero

y no ponen ni un duro en sus enmiendas para apoyarlo pues bueno en fin pues ante el desconocimiento por esta vez se lo vamos a dejar

se han quedado solos con el partido popular y ustedes de alguna manera están siendo cómplices de la estrategia del partido popular que lo único que quiere es entorpecer este proyecto y mire hasta la señora larrion que probablemente sea la posible

que haya apostado por este proyecto y que haya mostrado la voluntad de que salga adelante pues bueno

lo ideal sería siempre tener lo mejor de lo mejor pero quizás adecuando las actuales basta y sobra

porque apostemos por adecuar unas cocheras e intentar resolverlo que no creo que sea un parcheo señora lópez de ocariz que probablemente pueda ser una solución factible y que además sea una solución que no le cueste tanto dinero a la administración pública y por tanto no le cueste tanto dinero

en ningún momento he dicho que quizá con adecuarlas simple y llanamente sea posible

ni menos pero en fin lo cierto es que aquí todo el mundo sabía que había un problema todo el mundo era conocedor de ese problema todo el mundo sabía que las cocheras eran necesarias

para hacerlo materializable todo el mundo lo sabía porque todos somos más listos que el hambre pero resulta que se ha aprobado el convenio que se han aprobado los presupuestos

que sean un poquito más espabilados y nos hagan ver los problemas antes de que nosotros seamos capaces de verlos gracias eskerrik asko andueza jauna

pues señor andueza efectivamente los de gasteiz nacemos donde queremos en eibar o donde haga falta

sí una pequeña cuestión que bueno se pueden ver las cosas de diferentes manera

desde dos mil dieciséis pero también entiendo yo al menos lo veo así que se pueden hacer

lugar a diferentes convenios y que este es uno que trata un tema en concreto

pero no creo o yo al menos no lo entiendo que porque se haya cerrado

o más adendas pero señora lópez de ocariz tengo

también dudo de que se vaya a hacer dudo que se vaya hacer usted me reconocía que euskal herria bildu efectivamente lleva la legislatura posicionándose a favor de los principales

nosotros en aquel convenio que acordamos todos los partidos en diciembre de dos mil quince también porque aquello fue por unanimidad hemos seguido apoyando el convenio defendimos el tranvía al sur tal y como venía el plan de movilidad sí hemos defendido

sí y lo siguiente que nos vendrá es el estudio de alternativas de este oeste sí sí lo hacemos así pero también estoy de acuerdo con usted

desde luego si un ingeniero hiciera esta propuesta le digo que al día siguiente no está en el puesto de trabajo es cierto

es así y eso es lo que se está reclamando aquí se está reclamando y hoy creo que aquí en este caso es una reclamación

de que se pueden hacer las cosas aquí ahora y bien porque se van a tener que acabar haciendo y las vamos a hacer tarde y mal si efectivamente si creo que ese análisis coincidimos efectivamente señor becerra usted decía que si hoy no votamos a favor de la propuesta no sé si le he entendido bien de la del partido popular o no sé si me decía de la suya no sé aquí corríjame vamos a conseguir que no se incluyan las cocheras señor becerra no sé a cuál de las dos se refiere pero ninguna de las dos sabe usted perfectamente

es decir creo que todos compartimos la necesidad de las cocheras pero usted sabe que la paralización del convenio no supone que se incluyan y que su moción tampoco

las cocheras pero no vamos a paralizar el proyecto si lo tenemos muy claro

pequeño comentario pero muy breve lo de que la actuación de euskal herria bildu por ejemplo cuando renegociamos de la financiación público privada a la pública

para la ciudad de siete millónes de euros es decir hay determinados aspectos que se ha conseguido para sanear la ciudad dice usted que está absolutamente endeudada bueno tiene un presupuesto con dieciséis millónes de euros más nosotros creemos que

pero para nosotros la prioridad va a ser empleo y otras cuestiones a las que les hemos dado muchísima importancia y le vamos a seguir dando hay posibilidades porque la capacidad de endeudamiento anual

pero efectivamente creemos que se tiene que cofinanciar si eso es lo que estamos defendiendo señor tellería no tiene usted razón usted dice

que ustedes no acepten ahora las cocheras va a conseguir eso porque lo que se va a hacer hasta ahora es precisamente lo que nos han traído ustedes

lo que se diseñó desde el departamento del gobierno vasco es lo que se va a hacer y la contribución que debería hacerse desde el ayuntamiento que sería efectivamente

la ronda sur es lo que efectivamente ustedes ahora mismo van a dar portazo a que se haga

a que precisamente el alcalde pueda presentar como propio algo y esa es un poco la desgracia porque esa cuestión que es meramente municipal dice usted pero usted está contradiciendo

la nota de prensa que puede usted consultar del catorce de octubre de dos mil dieciséis con lo cual

decía el señor urtaran en este sentido el alcalde propondrá incluir la construcción de las nuevas cocheras en el proyecto las actuales están obsoletas que dice usted que ahora hay un informe que dice que no y el brt cuenta con una serie de necesidades técnicas muy concretas a las que debemos responder que dice usted ahora que no usted le está contradiciendo al señor necesitan más espacio y puntos de carga específico y sigue son ustedes los que están en el fondo haciendo lo que le acusaba

y eso es lo que no entendemos porque dicen que ustedes tienen un informe ahora que dice que no son necesarias las cocheras

no lo conocemos con lo cual cuando dice usted que este es un debate municipal será un informe que conoce el partido nacionalista vasco en todas las instituciones porque desde luego en el municipio no lo tenemos

con lo cual creo que aquí hay bastante más detrás y les vuelvo a decir se pueden arreglar las cosas bien y ahora o lo vamos a acabar haciendo

egun on guztioi primero voy a aclarar señora lópez de ocariz a usted no le he llamado mariachi en cualquier caso tampoco sería algo tan

estaría en el pp y si alguien les apoya serían sus mariachis justo todos los demás

ahora yo le pediría retirarse a usted le ha ofendido cuando usted retire que ha dicho que a mí me hace falta una terapia

aquí vamos a aclararnos las cosas usted en el fondo sigue manteniendo una tesis que hay que hacer

y yo he dicho lo que el alcalde ha dicho la semana pasada públicamente

pero todo lo que dicen es que el ayuntamiento no tiene dinero oiga eso no es una razón para hacerlo o no hacerlo

no será porque el anterior ayuntamiento se gastó todo no será porque el partido popular impulsó una reforma urgentísima de la constitución para minimizar el endeudamiento de las administraciones públicas por qué no tiene dinero y como no tiene dinero que lo pague otro por qué qué razones hay es que no lo pillo no termino de pillarlo ustedes se ponen todos de acuerdo en el fondo el acuerdo este es

vamos a pedir una cosa que no ha pedido el alcalde para dejarle al alcalde en ridículo ese es el modelo están haciendo política municipal

están trabajando sobre un proyecto concreto que va a salir sí o sí haya un garaje más grande o más pequeño mire

los de gasteiz no solo nacemos donde nos apetece sino que somos concejales donde nos da la gana

no pretendan ustedes ser el alcalde en vez del alcalde en el equipo de gobierno es el que decide lo que hay que hacer y cómo hay que hacer hoy hay aquí parlamentarios que también son concejales que en este foro actúan

no como portavoces municipales sino como portavoces de sus respectivos concejales sean parlamentarios en el parlamento por favor porque en política

porque la obsesión es enemiga de la sensatez la prisa obsesiva por alcanzar un objetivo transforma el razonamiento pausado y razonado en prisas burladoras de los argumentos y no pida que retire estas palabras señora lópez de ocariz porque no son ofensivas para nada

la obsesión le lleva a pasar de la reflexión a la irreflexión de la mesura

y hoy con este caso hemos podido observar cómo el pp de gasteiz el partido popular en vitoria

ha traspasado las fronteras de la razón de la lógica para sumergirse en las lodazales aguas de lo irreflexivo y de lo insensato

ser capaz de olvidar es la base de la cordura recordar incesantemente conduce a la obsesión y esta a la locura

que todavía no piensen en mayo del dos mil diecinueve y reconstruyan sobre ideas renovadas lo que tenga que llegar llegará

los espacios ni los tiempos espacio las cosas del ayuntamiento en el ayuntamiento el tiempo el debate electoral

ha presentado ya dos interpelaciones tres con esta y tres mociones y el objetivo de esta moción es volver a poner al gobierno vasco en el sentido de que se adopten una vez presentado el plan estratégico de apoyo y la infancia se adopten medidas efectivas de apoyo a las familias y se adopten también compromisos presupuestarios suficientes que permitan poner en marcha esas medidas en concreto y una vez que tenemos el pacto

sí solicitamos al gobierno vasco que remita de una vez por todas el cuarto plan interinstitucional de apoyo a las familias

un cronograma con un plan de actuación de desarrollo de esas medidas que se recojan en el plan por otra parte y viendo

ocasiones le pedimos al gobierno vasco

inmediata y sin demora el decreto correspondiente que permita materializar el compromiso también adquirido por este gobierno en relación a incrementar una anualidad las ayudas por el segundo hijo de dos a tres años uste dugu neurri

ez direla bete cuando empezamos esta legislatura nos encontramos que no teníamos el cuarto plan interinstitucional de apoyo a las familias todos ustedes recordarán que el tercero acabó su vigencia en el año dos mil quince

del impulso de una iniciativa del partido popular en relación a las políticas de familia

hemos visto también en esa evaluación y tras repasar

que muchas de ellas por no decir una inmensa mayoría en relación a las políticas de familia no se han puesto en marcha

y eso que el propio lehendakari en el pleno de política general de dos mil quince nos señaló que próximamente se remitiría esa

de familia estamos hablando del dos mil quince acabó la legislatura y no tuvimos esa estrategia

interinstitucional de apoyo a las familias como digo con ya medidas concretas en distintos ámbitos

vascas pero es más es que el propio lehendakari en la primavera del dos mil dieciséis en plena

plurianual de doscientos millónes de euros obviamente la estrategia de familia tenemos que decir que finalmente ha llegado se aprobó el dieciocho de enero ese pacto

y ha llegado tarde ha llegado con dos años de retraso respecto a los compromisos adquiridos también por el propio lehendakari tanto en la referencia

el señor lehendakari como gobierno de las personas adquirió en la precampaña

tampoco tenemos el decreto en el programa de gobierno va a incrementar que es algo que ya estaba previsto en el tercero plan de familia por lo tanto llega

el compromiso era materializarlo en el dos mil catorce el incrementar esa anualidad las ayudas

hijos por lo tanto hemos querido poner de manifiesto otra vez a través de la interpelación y de la moción berriro hau

el propio que le ha llevado a incumplir sus propios compromisos

por el segundo hijo y todavía no se ha podido materializar porque no tenemos el decreto correspondiente

y compromiso de este gobierno y nosotros entendemos que las políticas de familia deben de ser una absoluta

que se quieren adoptar medidas efectivas y compromisos presupuestarios suficientes para impulsar las políticas de apoyo a las familias pues nosotros queremos que ya de una vez por todas estos enunciados

en propuestas iniciativas concretas que den un impulso a las políticas de familia y que también corrijan

estructurales que tenemos en el ámbito de la natalidad y en el ámbito demográfico horrexegatik azkenean akordio batera heldu gara

sinatzea honen inguruan viendo las enmiendas presentadas a la iniciativa inicial del partido popular había

con la enmienda presentada por el partido nacionalista vasco y el partido socialista por lo tanto era entendible que pudiéramos llegar a un acuerdo

el otro grupo enmendante que era podemos pero sí que nos puso una condición

propiamente de esta iniciativa en concreta por lo tanto paso a leer el acuerdo

alcanzado la enmienda de transacción alcanzada entre el partido nacionalista vasco partido socialista

quiero también agradecer el esfuerzo de poder esta vez sí

haber llegado a un acuerdo pero como decía no era difícil porque la enmienda del partido nacionalista vasco el partido socialista reproducía en el primer párrafo íntegramente

y en el segundo párrafo pues prácticamente también era prácticamente bastante parecida

a elaborar y remitir en el plazo de cuatro meses a esta cámara

un cronograma de ejecución así como la consignación económica prevista por otra parte

recogíamos en nuestra iniciativa materializar de forma inminente el compromiso de incrementar en un cincuenta por ciento las ayudas a las familias con hijos e hijas y que se extienda progresivamente esas ayudas de los dos a los tres años y también a mejorar en el marco

un compendio de medidas que permitan mejorar y sobre todo arbitrar medidas absolutamente necesarias para dar

y también para subsanar corregir deficiencias que estamos detectando próximamente también vamos a tener un pleno monográfico en relación a la demografía y a las políticas de familia pero creemos que este acuerdo es un buen punto de partida para

ese debate desde obviamente una perspectiva mucho más amplia que lo que recoge esta iniciativa pero mostrar la satisfacción y el agradecimiento también a los grupos

eta ongizatea ere erdigunean jarri behar dira hace unos días una especialista en la materia recordaba un dicho que más o menos

zabaldu eta sakondu beharra dago reafirmamos y repetimos esto ahora bien

y con lo que yo misma manifesté en noviembre del año pasado porque a pesar de que quieran presentar en esta iniciativa

necesitamos un debate profundo y con el horizonte del debate monográfico

hacerlo la interpelación de la señora garrido en marzo en septiembre su moción de octubre la interpelación de diciembre la moción de hoy

porque pasan superficialmente por el tema queriendo hacer bandera de ello sin ir a lo profundo que nosotras entendemos que es a donde realmente hace falta mirar y ahí está la base del desacuerdo en medio de todo esto en enero y con una línea discursiva y propositiva muy similar al igual que las enmiendas presentadas a las iniciativas del pp

hoy al igual que entonces alto y claro reafirmamos nuestro apoyo a las ayudas

a todas las medidas que desde luego mejoren la situación de aquellas familias que tienen que sacar adelante a hijas e hijos haciendo malabares con el empleo con la ayuda impagable de abuelas y abuelos con el alquiler con una hipoteca interminable vamos adelante debatamos y propongamos claro que sí pero por favor con un poco de seriedad

que intentan hacernos creer que con una ayuda económica de cuatrocientos euros al año por el segundo hijo van a solucionar la vida de la familia van a proteger a la infancia y la adolescencia o van a

no es suficiente pero además es que tampoco es la solución la iniciativa de hoy como ya dijimos en marzo y en noviembre es parcial es incompleta es insuficiente y es incoherente con un partido que no aborda las causas

recorta derechos que también afectan a las familias a las que aparentemente se defiende así que no hay acuerdo bueno hay acuerdo entre ustedes pero nosotras

volvemos a defender la necesidad de servicios públicos integrales y referenciales defendemos que en ese pacto en la estrategia y en el plan

defendemos que las ayudas económicas sean contempladas en su totalidad

y que digan lo que digan unas y otras también afecta a las familias

se les sumen otras políticas que aseguren derechos y protección a niñas a niños adolescentes a personas adultas que los cuidan y protegen a todas las familias de todas las tipologías para que las personas que las integran puedan desarrollar vidas plenas porque las políticas para que las familias puedan vivir más y mejor tienen que ir más allá de simplemente las ayudas económicas o las declaraciones de intenciones hablemos de las dificultades para la emancipación de las y los jóvenes hablemos de las abuelas y los abuelos

hablemos de mujeres solas con empleos inestables y precarios de mileuristas con hijas e hijos a cargo hablemos también de cómo protegemos a la niñas y a los niños que viven en familias cuyos adultos están desempleados y no llegan y quieren

y no pueden romper tampoco la transmisión intergeneracional de la pobreza

de todas y cada una de las personas que las conforman porque para eso para eso para nosotras eso es hablar de familias porque hablar de inversión social es hablar de familias hablar de infancia es hablar de familias tomarse esto en serio para nosotras por lo menos

de todas de las niñas y los niños de los adolescentes de los jóvenes y de los mayores es poner en el centro del debate la situación global de las familias entendiendo que con una ayuda

la situación ni la vida de nadie de forma permanente y estable que es lo que se necesita hablar de familias para elkarrekin podemos es también y sobre todo hablar de personas no solo desde una visión utilitarista o finalista invertir en infancia y familia no solo es hablar en exclusiva del fomento de la natalidad por las consecuencias que para el mercado

cada día más los bajos datos de natalidad porque señoras y señores hay que mirar a las causas y hay que poner soluciones estructurales y no parciales y es por ello que hoy no vamos a apoyar esta enmienda que es parcial hay que pensar en por qué tener hijas e hijos hoy en día en euskadi te hace pobre hace que tu calidad de vida

que no están siendo posibles y que se ven como un horizonte oscuro e inseguro para muchas en el día de hoy el futuro es como la utopía de galeano

ni siempre es posible y a eso es a lo que debemos atender y sobre lo que debemos buscar y debatir sobre los que debemos entender los cómos sobre los que nos toca reflexionar y no proponer parches o soluciones parciales como los del pp

que solo buscan aumentar la natalidad y no mejorar las vidas de las personas por cierto sin contar con nosotras con las mujeres un pacto de hombres para decidir sobre un futuro que sin nosotras no es posible

hoy debatimos en este punto del orden del día sobre la adopción de medidas efectivas de apoyo a las familias en euskadi pero sin embargo esta iniciativa es muy similar a una moción presentada por el partido popular en el pleno de

casi igual a la del pleno del dos de noviembre también del año pasado sin embargo mi grupo parlamentario los socialistas vascos consideramos que esta iniciativa aunque vuelve a reiterar vuelve a reiterar en gran parte la última presentada porque

prácticamente ese punto se recogía ya dentro de la enmienda a la totalidad que se aprobó en el pleno de nueve la enmienda a la totalidad del grupo nacionalista vasco y grupo socialista que se aprobó en el pleno del nueve de marco con la abstención del partido popular y los votos en contra del grupo eh bildu y

que ya tiene fecha para su realización que es el veintiuno de marzo

vamos a tener la oportunidad de debatir más en profundidad sobre las medidas a adoptar en apoyo a las familias en nuestra comunidad autónoma de una forma mucho más amplia dentro de este pleno pero durante todo este tiempo avanzando desde entonces en esta última iniciativa todos los grupos hablábamos de la importancia de contar con la estrategia vasca

y de infancia en el último cuatrimestre del año pasado y contamos con ella en este periodo

definitivo se retrasó porque se consideraba que esa estrategia sería deseable que se pusiera en práctica con el mayor consenso posible porque

con el paso de los años y eso exige una estrategia global que no cambie cada poco tiempo que no sea cortoplacista sino que se mantenga y perdure para que los resultados sean los deseados

y que permita mejorar en las tasas de natalidad y que

se le diera la participación a las patronales a los sindicatos y otras organizaciones incluido el tercer sector y que esa estrategia debería de ir unida a un cambio cultural y social y eso

y eso precisamente fue lo que alargó el proceso un poco más en el tiempo

lo deseable es que precisamente esa estrategia como he dicho saliera con un consenso amplio para que se mantenga mucho más

familias y de la infancia se ha firmado el pacto vasco

firmado el dieciocho de enero del dos mil dieciocho con el apoyo unánime de las tres diputaciones forales de eudel y también del consejo vasco

ha sido el segundo paso en el desarrollo y todo este proceso va a culminar dentro del este cuatrimestre del dos mil dieciocho

y la infancia donde se materializará lo recogido ya en la estrategia de

también dentro del pacto recientemente firmado

de ejecución pero este compromiso ya se había recogido

de la iniciativa del partido popular porque ya viene recogido plasmado dentro del propio pacto vasco por las familias y la infancia y la propia

de empleo y políticas sociales ya lo había manifestado en ese sentido en unas jornadas recientemente celebradas y también en el pleno monográfico del dos de febrero es decir contaremos en breve con ese plan y también vamos a contar con la posibilidad de poder debatir

monográfico próximamente el veintiuno de marzo referente a este tema lo que es una realidad es que euskadi es la única comunidad autónoma que va ya por el cuarto

que no han realizado todavía ninguno y además es la comunidad autónoma que más partidas económicas destina a ayudas y somos la única comunidad autónoma en el estado que consideran estas ayudas a las familias como un derecho subjetivo y universal habiéndose mantenido

aún durante el periodo de la crisis económica y van a seguir aumentando más como viene recogido en la enmienda transaccional que va a ser hoy y que ya también se aprobó y se comprometió

como digo se han venido realizando políticas en esta línea en los últimos años pero nuestro grupo parlamentario está de acuerdo

hay que marcar las estrategias a seguir con el máximo consenso para que perduren en el tiempo y se consigan corregir tendencias en los años

que viene recogido también dentro de la estrategia vasca

y también viene recogido dentro del pacto recientemente firmado todo ello se plasmará próximamente en el cuarto plan de apoyo a las familias

no podemos hacer únicamente políticas que se ha demostrado que no funcionan por sí solas que son cortoplacistas sino que hay que avanzar

europeo el grupo socialista está también de acuerdo con ese planteamiento hoy en esta iniciativa volvemos otra vez a hablar de planteamientos asistencialistas

grupos parlamentarios casi todos los grupos parlamentarios en el debate del pleno de noviembre

reciente que teníamos que ir más allá porque evidentemente solo con medidas asistenciales no se puede resolver este problema esperemos encontrar al partido popular con miras más amplias también dentro del monográfico

a tener próximamente el veintiuno de marzo nosotros

y ese derecho subjetivo para todos vendrá de la mano de la construcción de este cuarto

de un sistema integral de protección social si lo hacemos dejará de ser solo de subvenciones por tanto nosotros lo que vamos a hacer hoy es apoyar

firmada por el grupo nacionalista el grupo socialista y el grupo popular porque es prácticamente igual que la enmienda a la totalidad que habíamos presentado a esta iniciativa

y los socialistas vascos recoge el compromiso ya

interinstitucional de apoyo a las familias vuelve a recoger también

e hijas y la única novedad es la de mejorar

a hijos e hijas bueno se da un pasito más y siempre

en profundidad en el debate sobre esta materia porque lógicamente como he dicho vamos a tener la posibilidad de entrar en ese debate mucho más profundo que es lo que todos tenemos dentro del pleno monográfico que se celebrará el próximo veintiuno de marzo

a las familias con retirar la reforma laboral por ejemplo tendría mucho más efecto que cualquier otra medida que se vaya a plantear en este momento eta

eta diario vascok esaten zuen que de momento no son más que palabras euskadi rediseña su política familiar y plantea un modelo más universal y amplio en ayudas

que debe concretarse en medidas esas medidas que mencionaba la señora sánchez

eta diario vascoko artikuluak berak aipatzen zuen que se está trabajando ya en un decreto que no será tan ambicioso como el pacto

que eso de pagar la propaganda a pachas nada que cada cual se paga la suya ezta

la del gobierno la tenemos que pagar entre todos eta hori

que el incremento a las ayudas a la familia es un compromiso de país el incremento de las ayudas en sí mismo se ha demostrado que no es efectivo simplemente eso no es efectivo entonces el poner otra vez el foco es el momento de poner el foco en otro tipo de políticas y nos lo decían el otro día

en las jornadas que se organizaron de la estrategia de familia y nos decía

izango ditugun ere proposamenak aztertzeko la señora guanche nos decía que la iniciativa repetitiva

porque nosotros hemos constatado una inacción de este gobierno en relación a las políticas de familias la propia señora kortajarena yo creo que

va tarde que era necesario haber actuado desde hace tiempo y sobre todo cuando los compromisos adquiridos estaban ahí y yo me estoy repitiendo demasiado con estos temas pero es que es así es que el lehendakari en el dos mil quince nos hablaba de una estrategia de familia que iba a llegar próximamente

vinculada a un plan que lógicamente que si no tenemos el plan no podemos ver esa plasmación de todas esas medidas con esos compromisos presupuestarios en los correspondientes presupuestos pero miren yo no estoy empecinada con las ayudas a las familias pero creo que todos los que llevamos esta área en el parlamento hemos leído

los informes del ararteko y las conclusiones y las recomendaciones de los informes del ararteko en relación a esta cuestión y en concreto al informe del ararteko en las políticas de apoyo a las familias en el dos mil catorce y este informe

desde un ámbito absolutamente integral coordinado también

que hay que mejorar las ayudas a las familias las ayudas directas en el sentido de converger con europa es decir estamos todo el día mirando a europa y luego no avanzamos en la línea de europa en las ayudas a las familias

pero es que no lo dice el propio informe del ararteko es que ya lo decía el tercero plan de familia

para nada además vamos de forma casi no contraria pero hemos avanzado muy nítidamente y en el avance que podemos hacer esta legislatura que para nosotros es un suficiente pero algo es algo y

abordar muchos más ámbitos que las ayudas por nacimiento indudablemente que sí pero es que es uno de los puntos en los que hace hincapié el informe del ararteko tenemos un problema de natalidad señora guanche pues es así la propia consejera en la respuestas a la interpelación nos hablaba del riesgo que supone

tasas de natalidad más bajas no solo del resto de españa sino de europa y hablamos de una bajada del veintidós por ciento del dos mil dieciséis al dos mil veinticinco yo creo que estas cifras

tienen que ser un signo de alarma lo suficientemente relevante para que a todos los

se nos enciendan estas alarmas claro me hablaba también el partido socialista iniciativas similares claro pero es que hemos visto

si al final hemos visto la estrategia y el pacto de familia pero es que con dos años de retraso

el cuarto plan el tercero acabó su vigencia en el dos mil quince y todavía no lo tenemos

de que en cuatro meses se remita ese plan yo creo que si ustedes ya tienen ese pacto

el propio informe del ararteko que era necesario que este gobierno ejerciera un liderazgo firme en relación a las políticas de familia eso es lo que le estamos pidiendo a este gobierno conformado por el partido nacionalista vasco y el partido nacionalista vasco y esa ha sido la motivación de todas nuestras iniciativas yo me felicito en el acuerdo de hoy creo que es un avance es un punto de arranque para poder abordar

y llegaremos a puntos de encuentro con aquellos que desde luego pongan en el centro del debate las políticas de familia el fomentar ayudas a las familias no solo ayudas sino cualquier tipo de políticas un impulso decisivo con medidas efectivas a la situación de las familias en el país vasco y que se corrijan y subsanen

que en este momento tenemos por lo tanto creo que este es un buen punto de partida yo quiero agradecer nuevamente a los grupos

el acuerdo alcanzado y lamento que no haya sido posible el acuerdo con el resto de los grupos pero creo que sinceramente es un avance es un avance importante el acuerdo de hoy y no entiendo humildemente por qué ustedes se desmarcan de un acuerdo porque creo que hay en esta materia muchos más puntos en común que las discrepancias que ustedes quieren

puntos en común se puedan demostrar y podamos llegar a acuerdos amplios con el gobierno acuerdos entre todos en ese debate monográfico que vamos a tener próximamente besterik gabe eskerrik asko

señora garrido he dicho que es repetitiva pero no pasa nada no pasa nada aunque podría usted

abrir la mirada de vez en cuando y plantear ya que estamos aquí

a otras cuestiones señor urrutia ha dicho usted que hay que hacer proyectos a largo plazo y no un dribling en corto estamos de acuerdo con eso

y estamos de acuerdo con que se ha manifestado un compromiso

garrido yo no niego la existencia de un problema pero sí niego que solo haya aparentemente una solución posible o un camino posible

para el aumento de la natalidad y no pasa nada quiero decir no estoy

criminalizando o negando que eso no sea algo que hay que abordar lo que sí sé es que solo es una parte de este debate y una parte del reto que tiene euskadi a día de hoy porque hay cosas que se podrían estar haciendo y no se están haciendo de facto entonces si ese compromiso es tan trasversal

por qué por ejemplo hay desde el año dos mil quince una recomendación del ararteko sobre incorporar el bienestar superior del menor en todas las políticas públicas y concretamente la política de garantía de ingresos y lanbide responde que esto atiende a una política sectorial y que no es su competencia por qué se planteó en el año dos mil doce un recorte porque estaban las cosas mal y estábamos en crisis y todas teníamos que hacer un esfuerzo pero a día de hoy

de las prestaciones sociales que son las que posiblemente menor

de hoy cuestiones que han aprobado y que han apoyado los tres partidos en distinto momento y desde distintos lugares por qué a día de hoy las haurreskolas no son gratuitas por qué a día de hoy no hay un planteamiento una reflexión seria en torno a la situación de unos servicios sociales que no tienen

por qué tenemos una tasa de emancipación de jóvenes de las más altas de europa concretamente a los treinta años

que supera los ochocientos euros al mes por qué no hablamos de madres y padres que están solas con sus hijos y cuyas tasas de pobreza duplican las del resto de familias sí yo entiendo que tal vez anunciando el pacto en la radio

anime a algunas personas a tener hijas e hijos y solucionen el problema yo sinceramente creo creo que son imprescindibles y ahí coincido con cosas que han dicho tanto el señor urrutia como la señora sánchez como la señora garrido que son necesarias las estrategias globales begirada luzea es necesario un debate profundo coincidimos absolutamente no solo con lo que ha trasladado la señora kortajarena sino con la proposición

monográfico consideramos que los acuerdos son indispensables pero para acordar señoras y señores todas tenemos que ser capaces de movernos y dialogar no solo buscando réditos políticos buscando legitimar todo lo que ya se está haciendo yo estoy de acuerdo con los planteamientos que se han hecho de la necesidad de medidas concretas de objetivos medibles y evaluables insisto y estoy de acuerdo en que es necesario definir un presupuesto y que este sea suficiente pero también entendemos y de esto

implica tener efectivamente ayudas económicas pero también políticas para una sociedad más justa

y más solidaria nosotras estamos dispuestas a trabajar nuevamente como ya hicimos en los debates pasados tendemos la mano para una revisión de las políticas actuales abordándolas desde una

integral y esperamos que en marzo en el debate monográfico tengamos oportunidad de profundizar en esto abriendo la mirada todas y todos sin resistencia simplemente abriendo la mirada

únicamente en un aspecto muy concreto que tiene que ver con el aumento de la natalidad besterik ez mila esker

ha quedado muy claro todo en la primera exposición

o el pacto de gobierno no está formado por partido nacionalista vasco y partido nacionalista vasco sino partido nacionalista vasco y partido socialista vasco

de todas formas con independencia de todo nosotros hemos firmado esta enmienda transaccional lo he dicho en mi primera intervención porque servía para recordar el compromiso del cuarto plan interinstitucional de apoyo a las familias

ya he señalado también en mi primera intervención que

vasco de familias y de infancia

había hecho referencia al mismo la consejera de empleo y políticas sociales pero bueno está bien que se recogiera compromiso dentro de la enmienda transaccional aunque el plazo que se marca dentro de la misma es aún más amplio que el propio dado por la consejera de empleo y políticas sociales con lo cual

de apoyo a las familias y a la infancia antes de que se termine el plazo marcado dentro de esta propia enmienda

recogía algo nuevo que era lo que la referencia a mejorar marco del cuarto plan de ayudas a las familias todo el apoyo referente a las mismas y que ya se recogía respecto a lo que marca el resto del punto en la enmienda que se aprobó

ahora contamos con la estrategia vasca de familias y el empleo contamos con el pacto también recién aprobado el dieciocho de enero de este año y vamos a contar próximamente como hemos dicho ya con el cuarto plan de apoyo a las familias y la infancia sería deseable que pudiéramos contar con ese cuarto plan de apoyo a las familias e infancia antes del monográfico porque lo

antes del monográfico no sé si será posible por el corto espacio de tiempo que queda hasta el veintiuno de marzo para celebrar ese

debate tenemos que ir evidentemente como todos los diferentes grupos hemos señalado ir mucho más allá que lo que son los planteamientos asistencialistas como he dicho yo también en mi primera intervención porque aunque está claro son un complemento

lo único que se realice porque por sí mismas está claro que no van a conseguir resolver el problema a futuro y como he señalado también en mi primera intervención es importantísimo realizar esa estrategia global que sirva dure en el tiempo que esa estrategia sea lo más consensuada posible para que también dure mucho en ese tiempo si tú estás cambiando las políticas cada dos por tres

a largo plazo en toda la estrategia que se debe de seguir

positivos esa estrategia tiene que ser estable en el tiempo para que con el paso de los años los efectos de lo que se ha acordado hoy se vayan consiguiendo

y vaya permitiendo así cambiar la dinámica que en este momento existe y que los estudios ponen

agradecer a los grupos que hemos firmado el acuerdo el esfuerzo realizado

hablar acordar dentro del monográfico que muy próximamente vamos a tener y vamos a debatir más en profundidad respecto

no es el único objetivo también lo es

ahora es evidente que para abordar eso esto no se aborda diciendo

y cada vez más y cada vez más no no es evidente que hay que afrontarlo con medidas transversales generales

yo creo que todos lo tenemos meridianamente claro

viendo su enmienda yo creo que es cierto que se aproxima más al nuevo tiempo que tenemos que afrontar y ahora que no nos escucha nadie le pido una cosa es básicamente la misma que le he pedido a la señora kortajarena y es que

por favor sean naturales nosotros tenemos voluntad de llegar a un acuerdo y no solamente voluntad creo que todos tenemos necesidad de llegar a un acuerdo

y por lo tanto a mí personalmente me gustó su enmienda y espero que no sea un texto cerrado sagrado

e intocable que sea un texto de trabajo a partir del cual podamos empezar a trabajar y a debatir

en esto que yo me he atrevido a llamar el ciclo nuevo y también le pido una cosa es una cosa que yo echo bastante en falta y que alguna otra portavoz en alguna otra materia me ha reprochado alguna vez

porque la verdad nosotros en ese debate en el que se nos pide que no nos pongamos de perfil no queremos hablar de políticas de natalidad eso es una perspectiva muy reduccionista muy reduccionista queremos hablar de políticas de familia y eso implica otra serie de cosas eso implica otra serie de cosas

tenemos un reto muy importante que tiene que ver con lo demográfico pero es un reto que tiene más que ver

tiene más que ver con el buen vivir que con la natalidad la natalidad seguramente se incrementará si somos capaces de traer hijos e hijas a un mundo que sea más justo

eso será una de las garantías para incrementar la natalidad eta begira guk oso argi dugu

gracias señora presidenta buenos días a todos y a todas no sé si vamos a ser efectivamente sobre todo los que y las que intervenimos en este punto reiterativos

que debatimos en el pleno anterior y se ha ocupado este parlamento y otras instituciones vascas sobre esta materia y me disculpan si en alguna cuestión me voy

a repetir porque todas conocen el debate que se produjo la semana pasada referimos cuál era la iniciativa presentada cuando tomé parte

de la proposición de eh bildu sobre una ley integral de memoria histórica y expliqué esta iniciativa nosotros pretendíamos hacer un camino común para todas esas formaciones políticas vascas que de verdad estamos comprometidas

políticas públicas de memoria y que lo hiciéramos en común

que decir que hemos llegado a un acuerdo amplio el partido nacionalista vasco y nosotras que presentamos la iniciativa junto a eh bildu y

que se ha requerido de la generosidad de todos los grupos y por eso debo de ratificar que todos nosotros lo que queremos finalmente no solo era hablar de aquellas iniciativas de políticas públicas de memoria que se han realizado por parte de las instituciones vascas como dice en la iniciativa desde los años ochenta

que se hayan presentado en uno u otro sentido por las distintas tradiciones políticas y fuerzas políticas del país hemos encontrado un camino común con ese objetivo de memoria y reconocimiento y reparación a las víctimas

teniendo en cuenta lo que se ha actuado y es a todas las propuestas que ha habido y voluntades respecto a la memoria histórica pero también intentando llegar a un consenso

fácil pero finalmente me quedo con que ha sido posible estoy convencida de lo que se ha firmado en nuestro acuerdo y de que todas hemos dejado

esta transacción y para sustituir ese nosotros por

son las víctimas del franquismo todas las personas que sufrieron que son las que de verdad requieren de todas esas políticas públicas de memoria incluida

vasca integral de memoria en ese sentido voy a decir rápidamente cuáles son los puntos es cierto que nosotras reconocemos todas estas iniciativas también

el incumplimiento de la ley de memoria histórica porque es verdad que

y el presupuesto a cero ha permitido o no ha permitido desarrollar todas las políticas

de dos mil siete pero también es verdad que esa ley llegó tarde con lo cual en esa iniciativa que existe en el congreso de los diputados esperamos acertar mejor

que pretendemos acertar con el mayor consenso también en la iniciativa que hemos presentado que parte de esa denuncia que parte de instar al cumplimiento de la ley que no se ha cumplido que parte también de un informe de gogora sobre todo en lo actuado en políticas públicas de memoria histórica y que también acaba

y tendrá en cuenta ese informe pero que también deberá contar como yo creo que todas todos hicimos referencia en el debate a las asociaciones memorialistas que han mantenido

de esta demanda mientras la política iba mucho más lenta

organizaciones históricas políticas y sindicatos y las opiniones académicas que sobre la materia existen en las distintas instituciones

me alegra especialmente el acuerdo sé que

sí que me alegra porque ha habido

y también ha habido mucha generosidad seguro que me decís que de unos más que de otros pero en lo que a mí respecta no puedo sino alegrarme de que estemos en este momento empezó mal pero espero que acabe bien porque el objetivo común yo creo que es compartida por todas las fuerzas políticas que han firmado ese acuerdo antes decía es verdad

que reiterar no está mal sobre todo cuando vas a volver

cosas nuevas en el futuro una vez que tengamos ese informe de gogora por eso insisto en que

en el camino iniciado para lograr esa ley es la que me permite

decir que todo lo que hayamos dejado en el camino unos y otras sea

lo peor de esa futura ley y logremos lo mejor con el mayor acuerdo político porque todos

del derecho a conocer la verdad de los que son víctimas de sus familias pero también no solo

y también de la española que le queda mucho por saber de lo que ocurrió en cuanto a la memoria histórica el esfuerzo del consenso que hoy tenemos confío en que se mantenga una vez tengamos el informe de gogora

empecemos entre todos a poder trabajar esa futura ley con la participación ya lo he dicho de las asociaciones memorialistas organizaciones históricas y todas aquellas experiencias opiniones académicas que nos puedan

también compartimos que hablar de memoria en ningún momento puede ser para la sociedad vasca y las fuerzas políticas vascas abrir

y al rencor y abrir por fin

que han vivido en silencio y han traspasado a sus hijos

de las instituciones en cuanto a lo sufrido desde el levantamiento del régimen franquista contra el gobierno legítimo de la república pasando por la guerra civil

régimen franquista insisto gracias es un buen camino espero también compartir en el futuro reconocer a las víctimas compartir los lugares y senderos de memoria en este país y evitar cualquier tipo de apología del franquismo porque al final la memoria nunca va contra nadie no hace daño a nadie

y solo agradece siempre el presente y el futuro del país que la trabaja gracias eskerrik asko

esfuerzo de consenso y acuerdo por parte de los grupos políticos y me alegro que en esta ocasión haya sido así también hayamos conseguido diferencias al margen acordar un camino compartido para evaluar las políticas puestas en marcha hasta el momento y planificar una mejora de las mismas incluyendo en su caso

y ofrezca un cierre legal a todas ellas nos corresponde por tanto unir y conciliar para que los instrumentos que en un futuro se puedan implementar resulten eficaces así que en vez de intervenir en este turno de en defensa de la proposición no de ley

lo hago en defensa de la enmienda transada con los grupos elkarrekin podemos y euskal herria bildu y quisiera hacerlo en primer lugar agradeciendo a ambos grupos

y su esfuerzo para la consecución de este acuerdo compartimos

también de analizar lo realizado hasta ahora y evaluar los instrumentos puestos en marcha con el fin de dar un nuevo impulso a las políticas de memoria en el texto que hemos acordado además de denunciar como decía la señora romero los reiterados incumplimientos de la ley cincuenta y dos barra dos mil siete

por parte precisamente de quien debiera ser el principal interpelado en esta materia y el principal encargado de ponerlas en marcha pedimos al instituto gogora la elaboración en el plazo de ocho meses en un plazo tasado por tanto de un informe que sobre la base de lo realizado hasta la fecha identifique las necesidades que las políticas públicas de memoria histórica pueden presentar y que cuenten con el más amplio consenso posible en el seno de su consejo de dirección

memorialistas y organizaciones políticas y sindicales históricas de la sociedad civil vasca del mismo modo nos comprometemos a que partiendo de dicho informe acometer en su caso una ley vasca de memoria histórica integral que recoja el trabajo de los movimientos memorialistas instituciones históricas y que tomen en cuenta la opinión técnica

en su proceso regulador y con esto que firmamos nos comprometemos y cumplimos nuestra palabra

y lo vamos a hacer desde el diálogo y la búsqueda de acuerdos en todo caso este gobierno y el grupo al que represento seguirá trabajando para que todas aquellas víctimas que fueron asesinadas

seguiremos impulsando y fortaleciendo la memoria histórica de este pueblo

de no repetición de los errores del pasado besterik ez eskerrik asko

bai egun on legebiltzarkideok yo también estoy contento señora romero un poco ronco

nos parece en cierto modo insuficiente como ustedes saben desde nuestra coalición hemos manifestado ya en reiteradas ocasiones la necesidad de elaborar una ley vasca de memoria histórica así lo defendí efectivamente hace una semana en esta cámara

rechazaron la posibilidad de iniciar la tramitación de la proposición

que además a nosotros nos pesaba porque se sumaba al rechazo que en su día nos encontramos por parte de pnv partido popular con la abstención de su grupo a la proposición de ley que nosotros trajimos para la reparación jurídica de las víctimas de la dictadura

sobre memoria histórica que eran rechazadas por estos grupos y rechazadas también por el gobierno vasco dos iniciativa que en nuestra opinión hubieran supuesto

y para con las víctimas de la dictadura y que fueron rechazadas por ustedes y de manera especial por el gobierno vasco con las valoraciones que hicieron sobre las mismas y yo no me cansaré de decir a pesar del acuerdo de hoy que en aquella primera ocasión se hizo además desde luego con unos argumentos absolutamente inconsistentes tanto en cuanto traíamos aquí una proposición de ley que era un calco de la ley catalana

hasta el partido popular y ciudadanos y que a día de hoy sigue sin haber sido impugnada en el tribunal constitucional por nadie y desde luego nosotros hoy vamos a

la conveniencia de una ley de memoria histórica integral creemos que es necesaria que es oportuna y que ya va siendo hora nuestro grupo no tiene desde luego problema en que se encarguen todos los informes que haga falta no solo a gogora sino a más actores como ha sido recogido finalmente en el acuerdo pero mi grupo tiene claro que necesitamos una ley de memoria histórica en euskadi y que hay voluntad mayoritaria en la sociedad y en esta cámara para llevarla a cabo sin que sea ningún informe

y no una cuestión técnica gogora tiene un papel muy importante y nosotros lo vamos a respaldar pero las cuestiones políticas las tenemos que dirimir aquí contando con la opinión de gogora sí pero también con la opinión como se ha dicho de otros actores como las asociaciones de memoria histórica las organizaciones históricas políticas y sindicales y diversos profesionales con todos ellos

que tengamos una ley vasca de memoria histórica de memoria democrática esto ha sido solo posible finalmente gracias a la mano izquierda que algunos han tenido y hemos tenido en el desarrollo de los debates y posiciones no solo esta semana sino desde que trajimos la primera iniciativa

y por eso anteponemos y vamos a seguir anteponiendo el objetivo de conseguir la ley que necesitamos

de estrategias políticas destinadas a ver quién se cuelga la medalla y esa es la razón por la que esta semana hemos hecho importantes esfuerzos para evitar que por tercera vez en lo que va de legislatura

sobre todo del partido nacionalista vasco evitara que saliera un mínimo acuerdo y por consiguiente hubiera una tercera ocasión en la que no sale

la verdad es que podría haber pasado hoy hemos estado a punto de que ocurriera y en nuestra opinión hubiera sido bastante grave el camino para llegar aquí el camino de los últimos meses ha estado plagado de reticencias y lo que es peor en mi opinión muchas de ellas inesperadas para la mayoría de la gente preocupada por esta cuestión inesperadas por el origen de las mismas

a nadie va a sorprender la actitud del partido popular contraria a desarrollar una ley de memoria histórica integral para euskadi pero lo sorprendente en todo este proceso

miren cuando yo llegué a este parlamento sabía que en importantes cuestiones políticas iba a confrontar con el partido nacionalista vasco y con el partido socialista de euskadi

en mis antípodas ideológicas sobre todo en cuestiones económicas y sociales y también

hondas diferencias ideológicas y económicas pero hay cuestiones políticas

o al menos así lo creía y lo sigo creyendo donde las posiciones son más coincidentes y donde no deberíamos tener especial dificultad en coincidir la memoria histórica la memoria democrática de nuestro país es una de estas cuestiones donde deberíamos tener intereses compartidos si atendemos a nuestra historia y a la historia de nuestro país

y todos hay cosas desde luego con las que no estamos de acuerdo

aprovechando la situación que algunos ocupaban en gobiernos y en diferentes ámbitos institucionales y comunicativos

lo estaba y lo estoy de que habría la suficiente coincidencia política en un tema como este y que no sería por lo tanto una de esas cuestiones de gran confrontación entre ustedes y nosotros en este parlamento mi sorpresa la verdad es que se viene dando

en especial del gobierno en el programa legislativo del gobierno para esta legislatura como ya dije también la semana pasada no había ni rastro alguno de la memoria histórica y tampoco lo hay en el acuerdo de gobierno entre partido nacionalista vasco y partido socialista a pesar de ser un tema importante estoy convencido para ambos políticos y por lo tanto en nuestra opinión lo que ha originado esta confrontación y la cerrazón ante la necesidad de una ley de memoria histórica durante algún tiempo se encuentra precisamente en la soberbia y en el miedo

y de los grupos que lo sustentan en esta cuestión y sobre todo que se pudiera visualizar que la oposición ha tomado la iniciativa en una cuestión tan sensible para ustedes y para nosotros

por esta razón tras rechazar la iniciativa de mi grupo y ante la noticia de que eh bildu registraba una iniciativa sobre memoria histórica creo que ustedes decidieron registrar

la que discutimos hoy para tener algo con lo que poder justificar un segundo rechazo el rechazo a la iniciativa de eh bildu creo sinceramente que eso es lo que ha pasado

salvar la cara al gobierno y para ello ha maniobrado tácticamente por encima de una cuestión tan sensible como la memoria histórica el argumento que ha puesto sobre la mesa

en nuestra opinión que ha buscado es que no sabemos si necesitamos una ley de memoria histórica hasta que gogora haga un informe nosotros sí lo tenemos claro ustedes no querían mostrarse partidarios de una ley porque su gobierno no la había plantado

a una ley de memoria histórica en una cuestión tan sensible también para ustedes

que no podemos saber si nos conviene una ley de memoria histórica hasta que lo determine un informe como si no tuvieran opinión política yo creo que la tienen

en cualquier caso como decía anteriormente nuestro grupo ha hecho un esfuerzo porque esta cuestión para nosotros es importantísima y hemos llegado a un acuerdo

que vamos a tener una ley de memoria histórica el pnv no ha querido ir más allá no ha querido aceptar explícitamente que la vamos a tener era su línea roja para llegar a un acuerdo una línea roja legítima pero que yo no puedo compartir no querían que el parlamento se pronunciase de manera más contundente

el parlamento vasco acometerá en su caso una ley de memoria histórica a nosotros les voy a decir

ese en su caso pero sabíamos que ese era el punto posible de encuentro nosotros creemos que hoy deberíamos haber dicho claramente el parlamento vasco acometerá una ley de memoria histórica pero hemos tenido cintura porque si no llegábamos a un acuerdo

nada de esta cámara y lo que es peor que hubiera supuesto un parón parlamentario ante la posibilidad de tener una

histórica en esta legislatura nosotros desde mi coalición elkarrekin podemos hemos decidido conjurarnos contra esto y por eso hemos llegado a este acuerdo

y termino ya que para nosotros tiene dos mandatos inexorables uno tenemos que impulsar una ley de memoria histórica integral en euskadi y dos

hacerlo como se ha dicho con las asociaciones de memoria histórica las organizaciones políticas y sindicales históricas y diferentes profesionales en la materia

de nuestra coalición con esa futura ley creo que ha quedado demostrado espero que podamos decir todas y todos lo mismo eskerrik asko

tardes señor hernández no va a ser resistencia lo que vaya a encontrar en el partido popular para hablar

haga por parte de quien sea habrá criterio criterio en relación con que si es legal

si es conforme a la constitución con que si entendemos que eso se puede hablar aquí o se debe de hablar y debatir en otros sitios pero no va a ser resistencia olvídense un poco de esos retintines siempre con el partido popular nosotros les hemos demostrado aquí que hablamos de todo de cualquier cosa y lo hacemos con seriedad y con rigor

no sé si en las cuestiones sociales las cuestiones económicas o en qué cuestiones

tratará de hacerlo con rigor y no con voluntarismo nosotros huimos del voluntarismo y nos centramos en el rigor así que no haga descalificaciones gratuitas porque no es así para nosotros esta iniciativa que presentan los grupos que apoyan al gobierno

instar a una institución a gogora a realizar las funciones que creíamos ya tiene atribuidas por ley

desde nuestro punto de vista una reiteración a la baja de algo que ya está reglado y regulado o sea esta proposición no de ley para nosotros es innecesaria o es un simple

los grupos no confían suficientemente en el trabajo de la institución o

pero no vemos muy clara en ese sentido la finalidad de esta iniciativa los grupos que apoyan al gobierno presentan una

sobre propios compromisos además asumidos en la búsqueda yo creo en relación con esta iniciativa de un contrapunto a la

de podemos y de bildu es una especie de pose de contrapunto

tanto la señora romero como el señor iturrate y con solvencia en esta cámara en pasados debates

además pues les ha podido parecer insuficiente el criterio del gobierno vasco y han querido hacer un sobreesfuerzo complementario parece ser a ese informe del gobierno vasco que se oponía por distintas razones alguna que nosotros también compartíamos a la toma en consideración de las iniciativas

yo creo que la iniciativa se divide en dos se divide en dos

y con el otro pues ya está arreglado ya está regulado ya está organizado incluso con cronogramas y con programas yo me tengo que referir a documentos a la ley cuatro barra dos mil catorce de creación del instituto

el plan de convivencia dos mil diecisiete dos mil veinte que también enmarca actuaciones que luego se van a reflejar en el programa de actuación de gogora dos mil diecisiete dos mil veinte

ya se podían estar haberse trabajado en ese tema incluso la propia institución podía estar trabajando en ese tiempo sin necesidad de una instancia de ocho meses o de un informe en fin ese tema yo creo que con voluntad

ficticio también con estas cuestiones y bastante pose le decía que la primera parte la de denunciar

son incumplidas se puede decir habría ejemplos

denunciar los incumplimientos por qué no se habla de otra manera por qué no se es más positivo cuando hay una falta de desarrollo cuando hay

no es la palabra tendríamos que estar denunciando permanentemente incumplimientos de las administraciones de este gobierno de todos los demás y de leyes de este parlamento o sea que en ese sentido yo creo que hay que afinar un poco más a la hora de arbitrar

el propio gobierno vasco en su criterio de la semana pasada no hablaba de incumplimientos hablaba de lagunas que puedan constatarse en relación

de que se puede instar a instituciones diversas a las que dependen de este parlamento y de esta institución o a otras a seguir avanzando

por donde se puede avanzar y si estamos hablando de la posibilidad incluso de una ley pues

pero bueno yo creo que no viene la hora de la denuncia sistemática cuando puede haber cosas que se pueden completar o terrenos por los que se pueden avanzar en lo demás es decir

pues para que la iniciativa por el grado de

contundente y un poco solvente lo demás entramos en la indefinición lo demás entramos en la indefinición en la instancia a

ya veremos con qué conclusiones pero es algo que

la ley cuatro barra dos mil catorce ya hablaba de la creación del instituto precisamente de la memoria

este parlamento creó ese instituto para eso para cuestiones como esas como la que estamos hablando supongo que sí

promoción políticas públicas de memoria agente activo de las mismas el artículo tres la finalidad las funciones con el artículo cuatro la coordinación de las políticas

desarrollo de la colaboración institucional donde se enmarcarían leyes como la que se está pidiendo

de consulta en políticas de memoria efectivas de políticas

se podía estar haciendo es decir que no tenemos que debatir sobre eso es decir y además

órganos que la componen que también son funciones de impulso a políticas de estas características

al que nos podemos referir pues el propio plan de convivencia y derechos humanos dos mil diecisiete dos mil veinte pues sí ya enmarca el ámbito de la memoria histórica

en relación con el proceso de clarificación de reconocimiento institucional vasco de la verdad de la memoria histórica es decir que ya hay marco y además ese marco todavía

otra posibilidad de actuación que es el tercer gran compromiso en

el plan de actuación gogora dos mil diecisiete dos mil veinte además que es exhaustivo el plan de actuación gogora dos mil veinte en el tema de la memoria es decir programa de actuación el cronograma las actuaciones

en la primera parte de ese plan de actuación en el marco general en la segunda parte en las orientaciones estratégicas

constatación de la realidad marcos de referencia y con una tercera fase que ya es la fase del programa de actuación en relación con los proyectos relativos a la memoria histórica

colaboración con instituciones aportación a la verdad difusión del reconocimiento a la verdad de la memoria histórica y reparación de las víctimas del franquismo estamos hablando de temas que ya hemos hablado que ya está concertados no hay que buscar acuerdos sobre lo que ya puede haber cauce institucional en ese sentido por eso mismo

hablaremos de lo que haya que hablar y de las iniciativas que se traigan y de las posibilidades de actuación que podamos hablar pero esta iniciativa es innecesaria señor iturrate usted empleaba un término el otro día

inmadurez en relación con algunas iniciativas pues esta iniciativa es un poco el contrapunto

algo que han tenido que acordar los socios del gobierno en relación con una actitud en este sentido pero yo le pido por favor

la de la legislatura pasada es decir cuál fue la de la legislatura pasada

iba a venir una ley la ley doce barra dos mil dieciséis me parece que se llamaba la de víctimas de motivación política un informe

al final de la legislatura llega una ley tenemos un mes para debatirla para aprobarla para hacer la ponencia para hacer las enmiendas y para todo eso traiga la ley ya si alguien quiere traer la ley de verdad una ley que va a tener un contraste constitucional

constatar como fue el ejemplo de la ley doce barra dos mil dieciséis por favor si hay

lo hagamos bien y no como la otra vez muchas gracias eskerrik asko barrio jauna

lege proposamenaren figura bera perbertitzen du nuestra iniciativa legislativa buscaba allanar el camino hacia el reconocimiento y reparación integral de todas las víctimas del franquismo por cierto víctimas que a día de hoy no acoge ninguna ley más aún víctimas que apenas tienen ya expectativas de que una ley les acoja queríamos poner en marcha el camino legislativo

transaccional porque precisamente entendemos que estamos más cerca de esta ley por fin parece que estamos en marcha y parece ser que el tributo para hacer una ley era hacerlo con las condiciones que impusiera el pnv podíamos haber invocado agravios para oponernos a este acuerdo

en el rechazo injustificado de nuestra ley para que hoy no hubiese acuerdo o al menos no tan amplio

la semana pasada para salirnos del acuerdo de hoy podíamos haberlo hecho pero no lo hemos hecho porque no somos así

pero nosotros no somos así no somos como ustedes

de que no había propaganda en nuestra iniciativa no había intereses aviesos en contra de nadie vuelvo a decir había una voluntad legítima

y sincera de abrir el debate el que hoy asumamos este esquema de trabajo es prueba definitiva de que eh bildu no tuvo segundas intenciones ni en esta ni en ninguna otra iniciativa será con sus

será sobre todo con sus condiciones señorías del pnv bien

las víctimas del franquismo las asociaciones que precisamente salían la semana pasada

tal vez vuelvan a ver luz al final

habrá un informe previo técnico que leeremos con interés y detenimiento y en ese informe aparecerá estamos convencidos la necesidad de una ley porque aunque sea totalmente de parte no imagino que un técnico un asesor

u otras nuevas actuaciones en pos de la memoria sean garantizadas por una ley sean dotadas de seguridad jurídica tengan respaldo y tengan también

que hagamos el desarrollo normativo de la ley cincuenta y dos barra dos mil siete efectivamente insuficiente e incumplida como se ha hecho ya en otras comunidades no puedo imaginar que ese informe

a tomar medidas efectivas de reconocimiento y reparación a las víctimas del fascismo

vendrá una ley en su caso como no hemos podido llegar más adelante en esta transaccional pero no se me ocurre en qué caso no venga

y pongo en conexión esta pnl que hoy aprobaremos con aquella otra pnl

solicitaba una comisión de la verdad y que considero que ambas dos constituyen un todo una decisión aquella que como la de hoy asume

muchas veces sentimos que los debates que tenemos aquí no tienen ninguna relevancia fuera y sin embargo los grupos memorialistas las asociaciones que trabajan con víctimas del franquismo recuerdan

en verla cumplida que las instituciones pongan en marcha un proceso de verdad y justicia algo que no se puede hacer si no es

y no podremos hacer esta ley si no contiene una comisión de la verdad

jada prest tal vez una carencia de esta

ahora consensuamos solicita un informe de ocho meses pero nada dice de los pasos sucesivos no podemos dormirnos no podemos dejarnos arrastrar por tentaciones dilatorias por una voluntad de postergar lo que es inaplazable

la iniciativa queda en manos del parlamento y hoy lo que me queda absolutamente claro es que el pp no estará en esta iniciativa

estará en su caso en esa indefinición

a esta transaccional el pse

pero hoy por hoy solo he visto en elkarrekin podemos una voluntad expresa de

con esta ley no podemos presentar otra propuesta de ley en este año porque resultaría reiterativo sin embargo de retrasarse el proceso que hoy votamos sin razón ni motivo eh bildu muestra su compromiso de consensuar al menos con elkarrekin podemos una propuesta de ley para ser presentada al inicio del siguiente curso legislativo a principios de

el emplazamiento sobre lo que piensa el partido socialista porque el otro día con ocasión del debate lo dije no lo voy a volver a leer lo único que dije entonces reitero ahora

obviamente la ley de autonómico la ley integral vasca que pudiera conseguirse en este parlamento

que podría proponer el partido socialista que la que podría y propuso eh bildu pero sobre la voluntad de que haya un marco legal de memoria histórica

mi partido no es el suyo como ha dicho antes las diferencias que tenemos no es eh bildu no es el partido nacionalista vasco y lo que hemos intentado encontrar es un camino común

hizo la ley del dos mil siete como es cierto que es el que ha propuesto la reforma de esa ley del dos mil siete porque señor barrio efectivamente esa ley no se ha cumplido

de acuerdo que esa voluntad de acuerdo se haga también con respeto a la propuesta de reforma y no le pase como a la

para acabar con la reforma laboral o para acabar con la prisión permanente revisable

continuas de tal manera que el congreso de los diputados no pueda abordar reformas

histórica también el congreso de los diputados donde efectivamente tienen las competencias para determinadas cuestiones se consiga en ese sentido hablo de la comisión de la verdad

la postura que tenemos está reflejada en muchas de las leyes autonómicas que se han aprobado no solo por nosotros sino en muchos casos acompañados de podemos y de izquierda unida hablamos de un consejo que pueda

con esa comisión de la verdad que sí quiere crear la proposición de ley presentada en el congreso de los diputados digo son las dos cuestiones que se han planteado no le voy a reiterar de nuevo lo que se ha lo cual es nuestra postura y

al que nos hemos encontrado por eso digo que no ha sido fácil esto y supongo que no será fácil tampoco el momento en que todas y todos nos sentimos a hablar del contenido de la ley porque ahí habrá

tenemos sobre el cómo llegar a hacer una ley yo decía el otro día lo importante es el qué no el cómo ahora dentro de ocho meses lo importante va a ser el qué

histórica y efectivamente hablaban del gobierno vasco yo creo que finalmente los consejeros y consejeras que están en el gobierno vasco con independencia de lo que digan los informes son políticos y políticas que representan lo han dicho

que han demostrado yo creo no voy a hablar solo

que tienen una voluntad con las políticas públicas de memoria histórica es el cómo no vamos a llegar al qué pero finalmente cuando lleguemos al qué señor hernández señor arzuaga va a hacer

mucho más importante que el que estamos llegando ahora no voy a decir lo que ya reitera la primera intervención

como reyes mate que sabe muchísimo más que yo de memoria histórica y de otras memorias

del mal tanto los nacis como los franquistas como todos aquellos y aquellas que han practicado la violencia
y han vulnerado derechos humanos de las personas muchas gracias eskerrik asko romero anderea euzko abertzaleak iturrate jauna zurea da hitza

que el debate de hoy se pudiese encarar por parte de algunos mirando al retrovisor en vez de al parabrisas delantero y

así ha sido como si esto fuese una segunda o una tercera vuelta de debates anteriores

que no se pudo cobrar en ocasión anterior no sé es una manera un tanto particular de encarar los consensos en todo caso

que es la expresión de la voluntad democrática y de la soberanía

es democrático en todos los casos en todo caso decía el señor hernández que ellos han tenido cintura que él ha tenido cintura

que si hablamos de cintura usted y yo pues lleva las de ganar aunque yo voy haciendo mis esfuerzos sobre todo últimamente pero en todo caso creo que

este tema y lo dije es que no estoy ocultando nada lo dije en el debate anterior nosotros consideramos que la ley de constitución del instituto

es nuestra ley de memoria histórica creo que tenemos una ley

a todas las políticas públicas de memoria histórica que queramos poner en marcha ese era nuestro punto de partida no sé qué tiene de malo

hemos escuchado a los demás grupos como hemos visto la posición de los demás grupos es evidente que tenemos que encontrar un camino eso no supone

estamos comprobando cuál es la opinión de otros grupos y estamos valorando y contrastando esa opinión pero eso no es un desdoro para este grupo parlamentario al contrario ni para el partido que represento

y estamos orgullosos de él nosotros no es que no queramos o nos neguemos a una ley y no voy a volver a hablar de los debates anteriores pero nosotros votamos no el que haya una ley de memoria histórica ni que sea bueno o no estábamos votando unos textos concretos y es evidente que las proposiciones de ley son instrumentos reglamentarios no hace falta que nos lo recuerde nadie y

un turno a favor y un turno en contra para que los grupos se posicionen a favor y en contra y tan legítimo y tan democrático y tan reglamentario es posicionarse a favor como en contra

ni eliminar la posibilidad de presentar proposiciones de ley

lo que hay que hacer es que para que una proposición de ley salga adelante tenga más votos a favor que en contra y para eso cuando uno

con dieciocho parlamentarios tendrá que buscar los que le faltan hasta treinta y ocho que son veinte más y con esa voluntad con esa misma voluntad que

espero que encaremos la proposición de ley que se presente si se llega a presentar si el informe considera que es necesaria una ley

debatiremos cuáles tienen que ser los contenidos y cada uno pondrá sus argumentos y los votos encima de la mesa que los votos no es una amenaza ni es una chulería

representando a las voluntades de la ciudadanía señor hernández usted y yo su partido y el mío compartimos

muchos años de historia contra la dictadura compartimos historias de sufrimiento y de lucha contra la dictadura y también hemos compartido políticas

públicas en materia de memoria histórica y estoy seguro que lo vamos a seguir haciendo pero eso no supone que tengamos que compartir todas sus opiniones

que ustedes no compartan los argumentos que dimos no es razón suficiente para que digan que no dimos argumentos a mí no me gustan los que ha dicho pero que no dimos argumentos que fue injustificada nuestra postura no en todo caso no estamos hablando de eso ustedes saben cómo se actúa

lograr acuerdos haciendo esfuerzos por ambas partes ustedes he reconocido el esfuerzo que han hecho para llegar a un acuerdo y creo que nosotros hemos hecho uno también desde nuestras posiciones iniciales con este tema

en un futuro próximo a partir de ocho meses podamos seguir avanzando en

del consenso y del acuerdo y lo que venga si tiene que venir no será una ley con las condiciones del pnv

el respaldo del pnv tendrá que tener el acuerdo del pnv y los acuerdos se forjan a través del diálogo y del consenso no a través de la imposición o de la presentación por sorpresa de iniciativas en este tema especialmente hemos dicho que vamos en serio con este tema hemos dicho que estamos comprometidos con lo que hemos firmado y vamos a cumplir la palabra de lo que hemos firmado pero lo que acordemos va a ser porque estamos convencidos que va a ser lo mejor para este país para la memoria de este país y para los derechos de las víctimas en este país

sí bueno primero quería dirigirme al señor carmelo barrio al señor barrio

sinceramente mi opinión que nosotros tengamos la opinión política que no es un prejuicio que es una opinión política basada en nuestra experiencia política

pueda ser reaccionario o pueda ser reaccionario a una ley pueda ser contrario a que iniciemos o a que tengamos una ley de memoria histórica integral pues es una posición política no es ningún agravio

lo que pensamos simplemente si finalmente tenemos una ley de memoria histórica que a nuestro grupo nos convence y el partido popular

en base a una experiencia es esa y no pretendía desde luego agraviarle sino

nuestra opinión respecto a la posición que en general mantiene

respecto a esta cuestión y que hasta en cierto modo no sé si puede ser comprensible teniendo en cuenta que en su partido

de aquel pasado pero desde luego no era mi intención agraviarlo sino explicar mi posición

no tanto por mirar al retrovisor porque sí sino porque creo que en un debate como este hay que tomar en consideración todo lo que venimos hablando estos meses

y nosotros teníamos la opinión sincera y tenemos la opinión sincera de que algunos movimientos algunas posiciones del partido nacionalista vasco tienen que ver con las cuestiones que yo he planteado antes y así lo creemos pero efectivamente nosotros miramos hacia delante y más en una cuestión como esta y además al igual que cuando yo llegué a esta cámara yo en una cuestión como esta

ni del partido socialista al contrario efectivamente usted ha dicho que tenemos una historia común

sus veteranos los veteranos veteranas de ellos

y nuestros veteranos hace muchos años lucharon en una misma trinchera

la misma represión que sufrió el conjunto de la sociedad y por lo tanto estamos obligados a ponernos de acuerdo en una cuestión como esta pero mi reproche que yo puedo entender que en un debate después de un acuerdo

pero es un reproche simplemente político no es tanto a que rechazasen

es un reproche porque yo creo que estábamos en condiciones creo que el partido nacionalista vasco está en condiciones y si no

estaría en condiciones de decir abiertamente

de memoria histórica integral porque faltan cosas por hacer porque yo creo que aunque usted diga que la ley del instituto gogora es nuestra ley de memoria histórica si esto es así es una ley

y por lo tanto yo creo y creo que en el fondo estamos de acuerdo

integral vasca de memoria histórica y efectivamente estoy de acuerdo con la señora romero que luego nos pelearemos políticamente

cómo tiene que ser esa ley yo me voy aquí

contento no es lo que a nosotros nos hubiera gustado al menos nos hubiera gustado que no apareciese ese en su caso yo ya le reconocí al señor iturrate que entendía que en estos momentos ese era el punto de encuentro

una ley de memoria histórica la ley de memoria histórica que necesitamos espero que trabajemos todas y todos en ese sentido y espero que finalmente la tengamos y creo que va a tener mucho que ver la voluntad de los partidos políticos y

la voluntad de algunas personas en los diferentes partidos políticos para que esto pueda ser así porque como ya he dicho en varias ocasiones creemos que es una necesidad

me he referido antes vamos a ver no hay que eludir ni vamos a eludir ningún debate y además vamos a ser constructivos cuando se llegue el debate como cualquier proyecto de ley

o en cualquier caso constructiva en relación con el planteamiento con los debates que se hagan

la legislatura pasada con la ley doce barra dos mil dieciséis que llegó en último momento y que tuvimos que vulnerar todo el trámite parlamentario hacer saltar por los aires todos los precedentes

y en un mes hacer una regulación ad hoc impuesta sin posibilidad de debates sin posibilidad de que se pudiera aportar yo entiendo que si alguien está en condiciones de presentar

de verdad y de verdad y con tiempo para que lo podamos debatir en cualquier caso vuelvo a decir estamos hablando de la actuación de órganos que ya tenemos

de regular de hablar de trasladar propuestas y políticas públicas sobre memoria es decir y además órganos que están presididos en sus consejos de dirección

esas iniciativas que hoy estamos hablando como algo tan nuevo tan nuevo podían haber sido también planteadas en programas de actuación porque el programa de actuación dos mil diecisiete dos mil veinte habla de muchas cosas de esas pero en cualquier caso no de instrumentos legislativos es decir vamos a ver si se puede trabajar desde luego con elementos y orientaciones estratégicas yo al señor hernández no me refería a agravios

cargo público de podemos fue uno de los últimos

está por ahí y podemos hablar de cualquier cosa tenemos que hablar del debate actual

las referencias de su partido no le digo a usted porque yo creo que usted sí que es una persona muy correcta y educada y desde luego nos critica nos llama reaccionarios

yo lo que le tengo que demostrar a usted es que yo le puedo criticar a usted y me puedo oponer a una iniciativa suya porque

o imposible de llevar a cabo y yo no quiero meter a este parlamento en un problema legal y esa expresión o ese planteamiento

a ningún planteamiento legal en ese sentido a ninguna ley de memoria histórica

tendrá las condiciones desde luego de entrar en el debate y en los planteamientos

sentir defensor de realidades legales o de realidades constitucionales que igual a usted no le gustan pero que yo tengo la obligación de defender así que en ese sentido

de rigor desde luego en lo que es la referencia a la descalificación al partido popular por sistema en estos temas porque usted sabe y todos saben que nosotros nos metemos en estos temas
sin eludirnos en ningún caso muchas gracias eskerrik asko barrio jauna

señora romero yo le agradezco su

a la ley pero dice que hemos establecido el camino común

es la propuesta de ley y

y eso era precisamente lo que queríamos haber puesto nosotros en marcha

un año yo creo que por algo y es porque ustedes han querido hacer esto bajo tras condiciones y bajo tras circunstancias que le sean más proclives pues a la situación que

el señor iturrate nos acusa de utilizar el retrovisor y el inmediatamente

estábamos votando unos textos concretos dice de eso nada de eso nada no estábamos votando unos textos estábamos votando a ver si los textos que presentamos

servían para abrir el proceso y usted además habló de mi texto efectivamente

dieciséis y del artículo veintiuno y del artículo no sé qué y empezó aquí a hablar sobre el texto podría haber planteado enmiendas podía haber planteado todas las enmiendas le podía haber dado vuelta completamente al texto de elkarrekin podemos o al nuestro

usted lo que hizo fue emplear una teoría de la conspiración que es decir que la iniciativa de eh bildu lo único que hacía era ir en contra del pnv

y el acuerdo firmado hoy y la actitud mantenida por eh bildu durante todo este trascurso

usted cuando trajo esta iniciativa esta pnl sabía que salvaría sesenta y seis votos no lo sabía yo no sabía cuándo traje mi iniciativa lanzada a la papelera usted no me llamó me ha llamado para

para llegar a la transacción gracias señor hernández gracias señora romero

nos consultó para presentarlo decía la presentó por sorpresa

hemos sido mucho más generosos de lo que ustedes fueron con las iniciativas que presentamos elkarrekin podemos y nosotros para que se pudiera abrir este proceso